legea unos presupuestos que se plantean como reto el relanzamiento económico de euskadi a través de la inversión

a estos capítulos lo que supone un incremento del cincuenta por ciento respecto a dos mil veintiuno en este sentido añado como me habrán oído señalar repetidamente que con el presupuesto para el año dos mil veintidós se pretende aprovechar una ventana de oportunidad pocas veces abierta por la comisión europea

por parte de la unión europea y que nos lleva a maximizar la inversión pública apurando los límites permitidos en situación normal

recursos que provienen del buen comportamiento de la economía y de la recaudación pero también de los acuerdos alcanzados en el seno de la comisión mixta

venimos de un presupuesto dos mil veintiuno que ya ha aprovechado la aplicación de la suspensión de las reglas de estabilidad y sostenibilidad financiera europeas

aprobar iniciativas inversoras que han sido adicionales a los presupuestos iniciales y que en zonas desfavorecidas y de modo extraordinario han venido a usar recursos disponibles en pro de un aumento del mejor esfuerzo inversor posible esta apuesta por la inversión en dos mil veintidós como seña de identidad presupuestaria tiene ya pues cierto recorrido junto con esta apuesta por la inversión pública el presupuesto del dos mil veintidós se caracteriza por su firme compromiso

un incremento de cincuenta y dos millónes lo que significa un aumento cercano al diez por ciento por otro lado el gobierno mantiene

de ocho euros de cada diez continúan destinándose al gasto social además la pasada legislatura iniciamos una apuesta inequívoca

que en estos presupuestos abarca el dieciséis coma cinco por ciento no se trata solo de financiar iniciativas explícitas destinadas a lograr la igualdad de género sino que esté presente en el conjunto de las políticas públicas

de presupuestos generales para el año veintidós el proyecto asciende a trece mil ciento ocho millónes de euros y el presupuesto operativo es decir el disponible

aislando los activos financieros es seiscientos noventa y cuatro millónes de euros mayor que en el proyecto del veintiuno es decir un seis por ciento mayor si bien es cierto que a estos como saben hay que añadirles los ciento noventa y cuatro millónes no incluidos en el fondo covid que podrían haberse destinado a disminuir la deuda y pasan por decisión de este gobierno a ampliar la capacidad de los gastos del departamento

millónes lo que significa un siete coma seis por ciento de aumento en relación al año veintiuno

bastante expansivo y el marco económico financiero que posibilita este crecimiento importante del estado de ingresos que permiten unos holgados gastos o al menos los que permiten que presentemos hoy este proyecto en relación con la primera cuestión debo señalar que el cuadro macroeconómico que se presentó con el proyecto de ley

conocida hasta septiembre en concreto se disponía de las cuentas económicas del segundo trimestre y de la información publicada sobre el entorno de la economía vasca con estos datos y las hipótesis de contexto se hicieron unas previsiones que

del seis coma siete por ciento para este año veintiuno y un seis coma cuatro por ciento para el año veintidós sin embargo

hemos actualizado el cuadro macroeconómico para el periodo veintiuno veintidós un nuevo cuadro macroeconómico que trae algunos cambios importantes en relación al anterior efectivamente el crecimiento estimado por el eustat para el tercer trimestre del veintiuno ha resultado ser sensiblemente inferior al previsto en el anterior escenario

el dato oficial ha sido del tres coma nueve por ciento parte de esa diferencia se debe a la hipótesis del entorno en especial al crecimiento de la economía española que pasa de una previsión del seis coma dos para el año veintiuno al actual cinco coma dos por ciento este punto

a la baja del cuadro macroeconómico vasco para el año dos mil veintiuno que pasa del seis coma siete por ciento previsto en septiembre al cinco coma seis por ciento actual

existe y es cuestión de tiempo que la oferta se ajuste a la fuerte demanda se trata por lo tanto de un retraso en la producción no de una debilidad del tejido productivo

trasladará su crecimiento al año veintidós eso explica que el nuevo cuadro macroeconómico se haya incluido una revisión al alza para el próximo año

ahora se anticipa un aumento del seis coma siete por ciento para el próximo año

ari da el encarecimiento se aprecia en el ipc y en el deflactor del pib

en el caso del deflactor en septiembre se esperaba una subida para dos mil veintiuno del uno coma cuatro por ciento coherente con los cálculos de los organismos europeos sin embargo en la actualidad se da por sentado que el conjunto de los precios aumentará por encima de esa cifra

una cifra que refleja la subida de los precios de consumo como saben el ipc en euskadi

y de los índices de valores unitarios que miden la evolución de los precios de exportaciones e importaciones que ambos crecieron con fuerza el segundo trimestre de este año el aumento del deflactor del pib en el actual

es decir el valor en euros de los bienes y servicios generados en euskadi en la previsión de septiembre del pib nominal el pib nominal crecía un siete coma nueve por ciento

un crecimiento nominal del nueve coma tres por ciento a este respecto conviene recordar que es

más que el real el que está relacionado con la capacidad recaudatoria que justifica los presupuestos del año veintidós por lo tanto el nuevo escenario macroeconómico recoge una revisión a la baja de las cifras del pib real y nominal en el veintiuno

de las del veintidós como resultado de un desplazamiento en el tiempo de parte de la producción prevista para este año hacia el próximo y por un aumento de los precios del conjunto de la economía en materia de empleo la revisión de las previsiones apenas trae cambios respecto a las de septiembre

y de once mil quinientos el próximo la evolución favorable del empleo tendrá su efecto

en el diez por ciento este año de media anual y bajará hasta el nueve coma dos por ciento el año próximo pasando a comentar

en lo referente a los ingresos las aportaciones de las diputaciones forales que representan el ochenta y cuatro por ciento del total de los ingresos del gobierno vasco ascienden a once mil tres millónes de euros

un catorce coma cuatro por ciento más en comparación

sin embargo con respecto a la preliquidación estimada por el consejo vasco de finanzas en la sesión celebrada el quince de octubre el crecimiento es de cuatrocientos cincuenta y dos millónes de euros un cuatro coma tres por ciento más

sin embargo por segundo ejercicio consecutivo no se han presupuestado los fondos que pueden llegar

dado que como quedarán afectos a la financiación específica de las actuaciones y proyectos

su habilitación se producirá a medida que se vayan ingresando o cuando haya compromisos firmes de aportación por parte del estado

así mismo también se prevé que los remanentes que al finalizar el ejercicio

se incorporen automáticamente a los presupuestos generales del ejercicio veintidós para su aplicación en los mismos gastos

por otro lado el acuerdo alcanzado en la comisión mixta del concierto

para el año veintidós como tasa de referencia el escenario incluido en los presupuestos dos mil veintidós es de seiscientos ochenta y tres coma dos millónes de euros de endeudamiento neto con unas amortizaciones de setecientos cuarenta y seis coma cuatro millónes

interesetan con estas cifras la deuda pública en el año veintidós no será superior

de concierto conocen ustedes de sobra las principales magnitudes del presupuesto por departamentos sectores y actividad y políticas públicas

solo cuantitativos salud vuelve a ser el departamento lógicamente que cuenta con el mayor presupuesto

lo que supone ciento sesenta y ocho millónes de euros más que en el año veintiuno educación por su parte

supone un incremento de ciento veintiséis coma nueve millónes de euros respecto al año veintiuno

adicionales el departamento de trabajo y empleo es el tercero en cuantía con novecientos treinta y seis coma dos millónes de euros aquí cabe destacar la inclusión de varios programas nuevos para garantizar la empleabilidad de jóvenes mujeres y mayores de cuarenta y cinco años

la mejora del empleo y la incidencia económica del ingreso mínimo vital ajustan la dotación presupuestaria prevista que asciende a los trescientos cuarenta y cinco millónes de euros

por su parte desarrollo económico sostenibilidad y medioambiente

de euros con un incremento global de ciento veintitrés coma tres millónes seguridad quinto departamento en peso presupuestario con setecientos veinticinco coma uno millónes de euros tiene un incremento de treinta y tres coma dos millónes de euros

con un incremento de cincuenta y siete coma seis millónes de euros igualdad justicia y políticas sociales dispondrá de quinientos veintiocho coma seis millónes de euros con un incremento de sesenta y siete coma uno millónes de euros como saben la principal novedad es que se incluye un nuevo programa el de instituciones penitenciarias por importe de setenta millónes de euros el departamento de cultura política lingüística crece hasta los trescientos veintidós coma cuatro millónes de euros treinta y dos coma seis millónes de euros más que en el año veintiuno y gobernanza pública y autogobierno

de nueve coma ocho el departamento de economía y hacienda manejará un presupuesto de ciento veintiocho coma seis millónes de euros con un incremento de cuarenta y uno coma seis lo más llamativo es la aportación de cincuenta millónes de euros al capital de la sociedad pública finkatze kapitala finkatuz a través del instituto vasco de finanzas

con veintidós coma cuatro millónes destinados a turismo y hostelería diecinueve coma nueve destinados a comercio y cerca de seis millónes a kontsumobide

de euros más que este año veintiuno por lo que se refiere

consta de cinco títulos cuarenta artículos catorce disposiciones adicionales

disposiciones finales y cuatro anexos que lo complementan lehen tituluan eta berrikuntza gisa lehen aldiz sartu da aukera

por otro lado se ha modificado la estructura presupuestaria de los presupuestos de los entes públicos de derecho privado sociedades públicas y fundaciones del sector público de manera que ya

y el de capital sino que en las correspondientes dotaciones y recursos se integran en

distinguiendo los gastos e ingresos de la actividad por un lado y las inversiones y las fuentes de financiación por otro lehenengo tituluaren barruan gainera

contempla en relación al contenido de los presupuestos diferentes disposiciones relacionadas con los estados de gastos

bi mila hogeita batean finkatutako ordainsariekiko geroratutakoak barne al igual que en el ejercicio anterior se incluye dentro de este título dedicado al estado de gastos un capítulo artículos veintiséis al treinta y tres relativo al next generation

al plan de recuperación transformación y resiliencia aprobado por el gobierno de españa en el mes de abril de dos mil veintiuno en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia establecido

no me resisto en este punto a hacerles partícipes de las reflexiones que en el departamento que dirijo está propiciando el modo en que el estado ha decidido gobernar la gestión

sería justo y apropiado decir a este respecto que lo que hace meses me habrán oído criticar por el atisbo

e impositivo se ha confirmado plenamente de modo que este ejercicio dos mil veintiuno la gestión estatal del mrr ha estado sembrado de inseguridad jurídica

y tomando a las autonomías como medios propios para ejecutar los proyectos a los que han dirigido unilateralmente sus políticas estatales con dinero europeo

creo que no se corresponde con lo que euskadi y cualquier autonomía merece y sinceramente espero que esto cambie algo y tengamos posibilidades de espacios de decisión conjuntos y para ello estamos trabajando con el gobierno de madrid de forma permanente y de manera estrecha en relación a los ingresos título tercero del proyecto de ley se consigna la cuantía de las aportaciones generales aprobadas por el consejo vasco de finanzas

y se recogen los coeficientes de aportación de cada territorio también aprobados por el consejo vasco de finanzas

por otro lado en el capítulo dos relativo a las normas de carácter tributario se procede a la actualización de las tasas de cuantía fija estableciéndose con carácter general un incremento del uno coma cinco por ciento de la cuantía

de la cuantía de la renta de garantía de ingresos en un porcentaje del tres por ciento con respecto a la cuantía

el establecimiento de una cuantía fija de doscientos setenta y cinco euros mensuales para la prestación complementaria de vivienda y para la prestación económica de vivienda

al gobierno para regular y disponer cuanto sea necesario en relación con los procesos de reorganización administrativa del sector público de la comunidad autónoma de euskadi

décimotercera y décimocuarta el proyecto de ley

recoge varias modificaciones en el texto refundido de la ley de tasas y precios públicos de la administración de la comunidad autónoma de euskadi

por su parte prevé una aplicación gradual del tipo de gravamen del canon del agua cuya nueva regulación entrará en vigor el uno de enero de dos mil veintidós

de las disposiciones legales vigentes sobre el régimen presupuestario de euskadi

su redacción en relación con la nueva estructura presupuestaria de los presupuestos de los entes públicos de derecho privado sociedades públicas y fundaciones del sector público de manera que

y el presupuesto de capital sino que las correspondientes dotaciones y recursos se integran en un presupuesto único bestalde aurrekontu orokorren likidazioa izapidetzeko

duen esku hartzea en correspondencia

en la disposición final quinta se incluye la modificación del artículo

vasco de cuentas públicas con el fin de prever que esta institución tras emitir su informe remita la documentación relativa a la liquidación junto con dicho informe al parlamento

ezaugarri nagusiak el pasado día dos de noviembre con motivo de la presentación del proyecto de presupuestos en comisión y a modo de conclusión hice una invitación al diálogo y acuerdo parlamentario para que estas cuentas salieran con mayores consensos que los provenientes de la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno

porque la actitud de este gobierno y de este departamento siempre ha sido incluso en situación de mayoría intentar atraer nuevos consensos que refuercen las políticas públicas que vertebran el presupuesto presentado y por ello señalé entonces que serían bienvenidas todas aquellas sugerencias enmiendas

que centradas en lo que son nuestras competencias y en un principio de realismo político económico fueran capaces de generar mejoras en las cuentas presentadas para que tuvieran

el ejecutivo ha suscrito un acuerdo con el grupo parlamentario eh bildu de manera que eh bildu no se opondrá al proyecto presentado por el gobierno y con su abstención a las cuentas para el año que viene viene indirectamente a avalar el planteamiento presupuestario

no ha sido posible hacer lo mismo con el grupo parlamentario populares vascos ciudadanos ni con el grupo representado por la coalición elkarrekin podemos por razones diferentes ciertamente las diferencias de planteamiento en el modelo de las cuentas a presentar a la sociedad vasca para el año dos mil veintidós que había entre este departamento y el grupo parlamentario

hacía irreconciliable cualquier tránsito para superar el relativo abismo que se observaba

así frente a un modo de afrontar el gasto anual desde parámetros muy justos a través de un ingreso no expansivo

este gobierno ha presentado un presupuesto claramente incrementalista para afrontar este momento económico aprovechando una realidad anticíclica en las reglas de consolidación fiscal

trufada de cuestiones aunque legítimas de naturaleza extrapresupuestaria e ideológica

de euros en políticas públicas por ellos elegidas y supuestamente prioritarias

para los ayuntamientos vascos aun con todo se atascaron de manera exclusiva en la rigidez del planteamiento que parecía

al no contentarla el gobierno en sus planteamientos políticos enumerados

de sanitarios tras la pandemia la no atención a un modelo educativo inclusivo o el rechazo a crear

de energías limpias de titularidad pública la sensación con euskal herria bildu con quien se ha llegado a un acuerdo para su abstención sobre las cuentas del dos mil veintidós

ante la respuesta a su primer documento de planteamiento negociador el gobierno respondió con una oferta económica similar a la de elkarrekin podemos orientada lógicamente

prácticamente ninguno de los seis planteamientos estrictamente políticos sino respondiendo de manera sincera pero tangencial a tres de ellos muy al estilo presupuestario pactado en navarra por cierto por encontrar el resto ajeno a una negociación de la naturaleza que se estaba manteniendo como les adelantaba al comenzar mi intervención

en los años veintitrés y veinticuatro por lo tanto se ha llegado a un acuerdo de corte estrictamente presupuestario

profundizar en políticas de gasto ya existentes en el proyecto gubernamental

para el año veintiuno redistribuir y aumentar políticas públicas de gasto

de euros en dos mil veintidós con destino a políticas sociales medioambientales o de juventud y garantizar subidas en políticas de investigación y desarrollo en algunos puntos porcentuales en lo que resta de legislatura sean cuestiones menores

es importante y por ello se ha hecho una oferta real y generosa pero lo verdaderamente relevante a todas luces es un cambio de rumbo en la voluntad de la coalición para con el tablero institucional de euskadi sus propias estrategias políticas y su manera de actuar

hace acuerdos y la falta de voluntad los impide que ello se haya dado con motivo de pactar una ley de presupuestos como les decía antes

en el que su concurso resulta irrelevante para la aprobación presupuestaria me parece igualmente trascendente creo que es un acuerdo muy importante una apuesta por la política útil

en los encuentros que hemos mantenido como espero que la coalición agradezca la sinceridad y la búsqueda de acuerdos que en todo momento ha mantenido el gobierno para que se sumen al consenso presupuestario aunque sea con la abstención por mucho que por su parte se acentúe una y otra vez

yo como mucha parte de la sociedad vasca interpreto que este de alguna manera también es el presupuesto de bildu ya que no están en contra habrá otras lecturas pero la mía termina aquí en la apertura de un camino y la antesala quizás de otros acuerdos

como instrumento de política económica un creo buen presupuesto para los tiempos que corren un instrumento que ha conseguido aunar voluntades y mayorías

un presupuesto realista realizable y abierto a nuevas incorporaciones económicas provenientes de financiación europea y nuevos acuerdos inversores interinstitucionales con los territorios históricos un presupuesto para la reactivación económica y la generación de empleo

un presupuesto que no se olvida de los sectores y personas que peor lo están pasando y que pone los recursos económicos públicos en manos y al servicio de euskadi

buenos días señorías hoy confrontan aquí diferentes formas de interpretar la realidad de esta región diversas opiniones acerca de los problemas y necesidades de quienes vivimos

diferentes opciones políticas y modelos de país y a nadie sorprenderá si de nuestro diagnóstico de la situación concluimos que la solución a los problemas de esta región

el país que es de todos los que estamos en este parlamento en vox consideramos que es mucho lo que hay que cambiar el enfoque general de estos presupuestos para la construcción

la sumisión a las agendas globalistas que generan problemas sin resolver los que de verdad existen

y que lejos están de resolver algo tan real como la violencia por ejemplo intrafamiliar

de ahí que solicitemos la devolución de estas cuentas al gobierno y de que nuestra enmienda a la totalidad tenga nombre y apellido que nuestra apuesta también para el país vasco sea la agenda españa que no es la suya queda claro con esa oscura alianza que han sellado con eh bildu

la prueba de que estos presupuestos son de ruptura y no de unión la abstención de eh bildu confirma que estos son los presupuestos para la construcción nacional

cierto que este giro histórico nunca figurará en los libros de historia

de eta para consolidarse como actor del teatro político sin pagar peaje

sin renunciar a su discurso violento e independentista

quienes han preparado estos presupuestos pueden vender apertura disposición al diálogo y consenso la batalla por el relato que todo lo contamina decía que son cuentas para la construcción nacional insistiendo en elementos fundamentales de su estrategia de lluvia fina para consolidar como realidad social aquello que nació

e i te be y su política lingüística de e i te be ya hemos hablado mucho un ente público que solo parece ser de las formaciones que gobiernan

secesionista con una marcada tendencia hacia el desprestigio e incluso el insulto

de corte español ciento sesenta y uno millónes de euros para información parcial para la imposición de lo vasco sobre lo español para representar a un país

parte de una falsedad que convierte en verdad incuestionable y la difunde además a los cuatro vientos por otro lado el euskera el idioma que ha sido bandera del independentismo violento que es un instrumento para la discriminación educativa social y laboral de quien no tenga los perfiles lingüísticos que ustedes imponen

es discriminación del castellano el idioma que sí es el de todas las personas que vivimos en el país vasco pero tiene un valor estratégico para ustedes es diferencia entre el vasco y el español es más distancia es más construcción nacional y qué decir de su nueva embajada vasca en parís más construcción nacional

de euros a los que necesariamente seguirán otros muchos y que solo servirá para reforzar esa interesada imagen de país con representación en el extranjero he de confesarles que me considero española y que me encanta además utilizar el nombre de españa el de mi país en este escenario

me encanta ver cómo les molesta un término que concentra todas las amenazas a su proyecto excluyente nacional vasco la alternativa repito es españa

la que vox dibuja en la agenda españa tiene además como único objetivo proteger a los españoles atender a sus necesidades y dotar a las próximas generaciones

igualdad prosperidad justicia y respeto por los valores y tradiciones nuestra agenda

dos mil treinta esa que impregna sus presupuestos y su acción política

empeñado en resolver problemas que no existen es la alternativa a esas políticas autoproclamadas como progresistas aunque en este caso progresistas es a progreso

yo mujer soy una firme defensora de la igualdad de oportunidades y derechos

defensora de la igualdad también en deberes ante la justicia en cualquier escenario de la vida y no puedo comulgar con el victimismo interesado que rezuma esa política transversal de género

en irekia podemos leer estas políticas que se llevan el dieciséis coma cinco por ciento

ahora eso sí estos presupuestos como los anteriores son lo más de todo

los más audaces los más necesarios los mejores los únicos posibles verdad señor azpiazu propaganda y más propaganda porque para empezar

a la hora de elaborar la enmienda de totalidad de vox actualizamos las cuentas en vigor al mes de septiembre

es prácticamente nulo además anuncian a bombo y platillo que ocho de cada diez euros están destinados a políticas sociales

son más de lo mismo insistir en lo que ya se estaba haciendo

extremadamente condicionado por la crisis sanitaria y la gestión que este gobierno ha hecho de ellas son cifras que se sustentan en estimaciones económicas que penden de un hilo y que se sustentan en más carga impositiva y en una creciente deuda pública

los mayores ingresos fiscales se traducen en subida de impuestos y la incorporación además de algunos más como los verdes más presión menos poder adquisitivo y aquí no hay magia posible por cierto cada vez me llama más la atención su obsesivo gasto

de adultos la subvención por ejemplo a medios de comunicación para el uso del euskera las ayudas a medios de comunicación que publiquen en euskera

financiar por ejemplo también sindicatos para entidades de todo tipo y condición cuya única aportación social es

millónes de euros para el instituto vasco de la mujer que solo llega a las mujeres que trabajan en emakunde introduciendo la perspectiva de género en todo recoveco posible tenga sentido o no a mí jamás me han llamado para interesarse por el buen trato que recibo a diario en este parlamento vasco y podemos hablar también del ararteko del instituto gogora

y vuelvo al inicio de esta intervención a esos pactos con eh bildu en esta cámara y en madrid pactos para borrar el pasado criminal de eta y su brazo político

homenajeaban en la vía pública a asesinos en serie salidos de prisión

menos años que muertes han causado no hay más gasto por ejemplo para prevención

pretenden ocultar para actuar contra las nuevas formas de delincuencia que nacen y crecen en este mundo de las nuevas tecnologías

son cuentas para justo lo contrario para incrementar diferencias y separar a esta región y a su gente del que es su país

menos aún de su aliado de última hora vox no se va a contentar con unas pocas monedas con un par de arreglos superficiales porque no hay quién arregle estas cuentas este proyecto de presupuestos solo se arregla devolviéndolos al gobierno porque sí señor azpiazu estamos en las antípodas de su presupuesto y también por supuesto

sí gracias presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías señora martínez

como enmienda de totalidad a los presupuestos de euskadi la transposición parcial de la enmienda a la totalidad de vox para los presupuestos generales del estado

el corta y pega aquí del punto siete de su enmienda en el congreso de los diputados que se titula anteponer las agendas globalistas plasmadas en la agenda dos mil treinta a los intereses de españa y de los españoles y a partir de ahí el contenido de su enmienda de totalidad a los presupuestos de euskadi

parecidos y similares a los propuestos en contra de los presupuestos del gobierno de españa

y lo que vale para el estado pues también vale para euskadi jalean en su discurso la xenofobia

a los cuatro vientos desde el populismo y la demagogia más rancia señora martínez contra su enmienda a la totalidad está la constitución española en dos artículos la constitución española desmonta todo el argumentario en el que ha basado su enmienda y su discurso en el día de hoy

que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y a la solidaridad entre todas ellas y el artículo tres en su punto uno el castellano es la lengua española oficial del estado punto dos las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas

y punto tres la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de españa es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección y estos presupuestos de euskadi para dos mil veintidós son unos presupuestos expansivos e inversores

reivindican oportunidades de presente y de futuro para toda la sociedad vasca y plantean acciones y programas para reforzar las políticas de género

a la igualdad entre vascos o españoles como ustedes pretenden para los socialistas vascos la política fiscal no es un expolio a la ciudadanía vasca ni la agenda dos mil treinta propone la destrucción de las clases medias o liquidar la soberanía de las naciones ni la desindustrialización ni plantea una religión climática ni ataca a la familia ni a la vida ni a las raíces comunes de occidente

en contra del ideario de vox y las partidas cuya supresión ustedes pretenden y reiteran en casi todos los epígrafes de su enmienda lo mismo sirven para un roto que para un descosido porque mire proponen suprimir

para lograr la igualdad entre españoles para conseguir la unidad de españa para conseguir empleo para conseguir salarios dignos

y la solución al problema sanitario todo todo eso con una con la misma partida la supresión de una partida presupuestaria solventa todas esas cuestiones hemos logrado

todo un amplio abanico de cuestiones y vox dice que tiene un modelo alternativo pero no presenta

que lo proponga o que lo corrobore los socialistas vascos votaremos en contra de su enmienda a la totalidad porque su participación en la política pretende debilitar la convivencia democrática

de las políticas públicas pretende socavar el estado social y dinamitar el estado de derecho y su interés en el debate presupuestario del año pasado

ha sido impugnar el sistema democrático porque no comparten sus reglas porque no comparten el sistema autonómico y porque en definitiva desprecian la política los socialistas votaremos en contra de la enmienda a la totalidad de vox porque su intervención de defensa y la propia enmienda trasladan un mensaje de odio

en una sociedad como la vasca y la española que son sociedades libres y democráticas y los socialistas vascos defendemos estos presupuestos porque no vamos a dar

en la conquista de derechos y de libertades de la ciudadanía ni de la ciudadanía vasca ni de la ciudadanía española y en vox tienen que aprender que en euskadi en españa cabemos todos cabemos todas y que hemos decidido convivir en paz la visión de la sociedad vasca que vox pretende

que se pasan de frenada y no resultan creíbles señora martínez quieren imponer una visión catastrofista una visión negativa sobre todo y sobre todos sus valores y principios se basan

la ley del más fuerte y eso va contra el fortalecimiento de la democracia va en contra de la redistribución de la riqueza y va en contra de construir una sociedad vasca justa y equilibrada vox no está dispuesto a colaborar en la recuperación justa de euskadi porque no creen en ella porque luchan contra ella

porque la recuperación económica de euskadi les perjudica y no les resulta rentable ni política ni electoralmente ustedes van al trazo grueso

pasan de informes de estadísticas y de datos que exponen lo contrario a sus soflamas solo interesa la manipulación y contraponer el nacionalismo con más nacionalismo y dibuja usted señora martínez

intolerancia machismo y un nacionalismo

nos ha insultado directamente a todos los de vox nos ha llamado xenófobos cómo que no me está diciendo que no xenófobos antinacionalistas bueno una serie de cosas en las que tampoco voy a entrar porque no es el momento de entrar al debate de este tipo de situaciones y no es algo que me caracterice dicho esto sí que le voy a decir que en vox tenemos la misma ideología el mismo pensamiento y la misma actuación en todas las comunidades autónomas no tenemos feudos ni tenemos reinos de taifas y en cada uno actuamos de forma diferente eso sí que se lo quiero dejar muy claro pero lo que sí que es evidente es que llevamos ya muchos años de lluvia fina para hacer real un supuesto sentimiento nacional de la ciudadanía vasca

en la educación en la comunicación en el sector primario más reciente también en la gestión de la pandemia podríamos estar de acuerdo incluso con algunas partidas y con otras

pero el problema es de fondo porque estas no son cuentas que pretendan una mayor conexión entre vascos y entre el resto de españa y usted lo sabe ni atisbo de solidaridad con el conjunto de españa ni se reconocen las bondades que el paraguas de españa

euskadi el egocentrismo que emana de este proyecto de presupuestos solo es comparable al de la visión de la región que da e i te be en sus diferentes espacios el centro del mundo

pero sin españa ustedes no serían absolutamente nada sin la constitución española como usted muy bien ha recordado ni tan siquiera existiría el gobierno vasco ni ustedes serían diputados en el parlamento vasco sencillamente porque no existiría y por eso le insisto la solución para los problemas de estas regiones es más españa

en asuntos nacionales que a todos los aquí presentes y a todos los vascos además nos afectan hablaba usted de que no habíamos hecho enmiendas claro que no

la educación del señor azpiazu a la hora de contactar con vox fue manifiesta por lo cual como usted comprenderá ese juego no va con nosotros ese juego no es para vox por otro lado he de decirle que dice que no resulta creíble nosotros

pero habla usted de creíble de que vox no es creíble en sus propuestas pero por dios

recuerdo que dijo hasta cinco seis siete ocasiones que no pactaría con bildu

gracias presidenta señora martínez la que no se ha leído la enmienda de vox en el congreso de los diputados es usted porque mire es el punto siete

literal párrafo a párrafo literal miren los socialistas vascos votaremos no a la enmienda a la totalidad de vox porque rechazamos de forma radical

que niega la realidad plural de españa que niega los principios fundamentales donde sustentar una convivencia plena entre diferentes hacer política desde el odio no va a servir de nada a vox ni a la ultraderecha

frustración y las socialistas con ciento treinta y cinco años de historia apostamos por un proyecto en el que quepamos

sin excepción así hemos sabido construir un modelo antagónico al que ustedes proponen hemos luchado y seguimos trabajando por un modelo de país

y para eso están estos presupuestos no han planteado en su enmienda de totalidad ni una sola solución o propuesta para afrontar la recuperación económica y social de euskadi ni de los retos de la sociedad vasca en esta nueva fase de la pandemia no plantearon una solución para ninguno de los retos en la fase de resistencia de la pandemia

al gobierno para intentar aclarar nada por eso van de antemano contra estos presupuestos ya no se trata de que hagan enmiendas parciales es que no han hecho ni una pregunta es que no se lo han trabajado señora martínez así de claro por lo tanto no pretenden ustedes ni siquiera

o afrontar las transformaciones que ya están llegando a vox no le gustan estas cuentas porque estos presupuestos son una vacuna contra el totalitarismo que promueve su enmienda y su discurso estos presupuestos son presupuestos realistas que nos posicionan bien ante los retos de futuro al que hay que mirar con respeto

para los socialistas vascos el gasto social señora martínez nunca va a ser un despilfarro

a vox eso de la emancipación y el derecho a la vivienda les viene grande y ustedes no comparten un estado social fuerte no comparten los servicios públicos sobre los que descansa

del modelo autonómico y vamos a votar en contra de la enmienda de vox porque los socialistas defenderemos estos presupuestos de euskadi como esa herramienta para combatir el populismo

y hay que dar oportunidades de salida de la crisis a la sociedad vasca usted en su discurso ha pretendido visibilizar unos presupuestos ajenos al desarrollo de una sociedad vasca

y transformaciones que están promoviéndose en europa y a las que desde euskadi aspiramos y en las que estamos dispuestos a trabajar como retos de hoy para tener un futuro cierto

su enmienda a la totalidad a estos presupuestos para dos mil veintidós

reduzcan la presión fiscal a los vascos a las familias a los autónomos a las empresas vascas impulse un gran acuerdo con las diputaciones con los ayuntamientos

se lo digo esto porque es un clamor en nuestra sociedad por eso debemos comenzar hablando de ello

lo que hacen tantos gobiernos de nuestro entorno y exactamente lo contrario de lo que ustedes están haciendo a pesar de los récords de recaudación

solicitando la devolución del proyecto de ley al gobierno porque la reforma fiscal es la primera medida para impulsar una recuperación sólida consistente una medida pendiente una medida pendiente desde la pasada legislatura que ahora tiene carácter urgente y para la que disponemos de un instrumento tan poderoso

señorías la salida de la crisis generada por la covid diecinueve exige reducir la carga tributaria de familias y empresas ustedes presentaron este presupuesto

pero se olvidaron de que todos esos récords se logran con un récord de impuestos es decir los bolsillos de los ciudadanos su gobierno de hecho sube tasas y tarifas para el dos mil dos

pone en marcha la aplicación del canon de agua ese canon con repercusión directa de subida en las facturas de todos los hogares

no es la vía para la salida de las crisis como tampoco lo es centralizar los recursos este año con una nueva ley de aportaciones en vigor

el setenta y uno por ciento del total de la recaudación sigue incrementando su participación más de siete de cada diez euros van a pasar a sus arcas lehendakari ese planteamiento cada vez más descaradamente centralista hace imposible que las diputaciones forales como titulares de la competencia fiscal una reducción de la presión tributaria hace falta por lo tanto el compromiso del gobierno vasco desde un respeto mayor a la autonomía foral y municipal para impulsar la reforma fiscal por ahí tenía que haber comenzado desde nuestro punto de vista la elaboración de estos presupuestos devolviendo recursos a otras instituciones

de hecho con esta premisa de impulso de la reforma fiscal nosotros le ofrecimos negociar el apoyo a los presupuestos

que no supondría una merma de recursos les planteamos por escrito las bases para ese acuerdo presupuestario es decir nuestro grupo pp ciudadanos se mostró abierto

tratábamos de lograr el presupuesto que los vascos necesitábamos y necesitamos para dejar atrás la crisis recuperar el empleo garantizar el bienestar de nuestros conciudadanos y hacer los deberes ante un futuro que no va a ser fácil para nadie pero fue imposible

su gobierno señor urkullu mostró la misma receptividad que la más dura piedra caliza del duranguesado

pactos miméticos a los que secundan en madrid y que suponen el ensayo de mayorías alternativas a la que representa el pacto con los socialistas vascos en todo caso

la puerta al pacto con bildu usted señor urkullu les abren las ventanas de par en par

no es la primera vez es cierto porque algunos tenemos muy presente la batasunización del pnv en el pacto de estella

nada bueno trajeron para los vascos aquellos pactos y nada bueno cabe esperar tampoco de este porque hoy como entonces la parte más importante de este pacto con bildu

creemos que el pacto con bildu es un pacto para la imposición la exclusión la ruptura que de momento se ensaya en los presupuestos pero que puede tener otro recorrido desgraciadamente

a subidas de impuestos y otros tributos pero creo que nos acordaremos de este pacto por ejemplo

y también cuando haya que abordar la reforma de la ley de la escuela pública vasca porque sus nuevos socios pretenden ignorar el fracaso de la imposición lingüística durante tres décadas

que el supuesto nuevo estatus y la puerta abierta a la independencia

como pretendida autodeterminación vuelve a estar en la boca de tantos portavoces del pnv

y en el aniversario de la constitución todo ello lógicamente supone imposición de radicalidad nacionalista exclusión de la mayoría de vascos discrepantes y ruptura con el vigente marco constitucional y estatutario es decir ruptura de la convivencia entre vascos

la posibilidad de constituir una nueva mayoría nacionalista motive la posición de bildu ante los presupuestos del año dos mil veintidós mucho más que el apaño contable

pero estamos ante la extensión a euskadi bajo el liderazgo del pnv de pactos existentes

como pretenden alejando el fantasma del pacto de izquierdas o simplemente contribuyen a su legitimación como alternativa en todo caso señores del gobierno señor

no altera la esencia del presupuesto un presupuesto en el que han preferido olvidarse de los ciudadanos y también de la realidad para presentar unas cuentas a su conveniencia

algo así como si el señor sánchez tuviera que presentar y defender los presupuestos en euskadi lo digo así

y se basa en previsiones desfasadas ni la recuperación es tan fuerte como podía parecer hace unos meses ni han tomado en cuenta las circunstancias económicas y sociales

sus previsiones es ya papel mojado han pasado muchos meses y ustedes pretenden que todo siga igual no es cierto

sus presupuestos la documentación que nos han remitido son mero ejercicio voluntarista sin anclaje alguno con la realidad

económicas y financieras todas ya incluso hasta el propio gobierno del señor sánchez todas salvo ustedes han revisado a la baja las previsiones que hacían

o de demanda interna todas bbva funcas banco de españa comisión europea fondo monetario internacional hace diez días

y a finales de octubre en la memoria de los presupuestos nos decían que todos los organismos

internacionales están revisando al alza las previsiones del crecimiento falso es más señalaban a la demanda doméstica a los hogares en particular

del crecimiento más falso todavía porque ese motor ya con los datos a treinta de septiembre

en negativo como se ve cualquier parecido de sus cifras con la realidad es pura coincidencia no han tomado en cuenta para corregir sus previsiones y por tanto sus presupuestos

o el bloqueo de las cadenas de suministros mucho menos

que crea cada nueva cepa de coronavirus ni el efecto que todo ello tiene sobre la inflación

sin actualizar ese cuadro macroeconómico que les decía porque hay riesgos evidentes que han despreciado no han prestado la mínima atención a lo que sucede en nuestro entorno

de forma que se eviten recortes bruscos en el futuro cuando la realidad se imponga al cuento del oasis vasco por lo tanto lo que nos traen hoy a debate

de verdad es este el instrumento de gestión de las políticas públicas de su gobierno lehendakari estas cuentas del gran capitán para el dos mil veintidós son la traducción económica de su política para el próximo año se lo digo porque hay que pensar también y preguntarnos

cómo afrontarán los retos de futuro porque ese es el escenario lo saben como lo sabemos todos

ya lo sabemos y dicen los fondos europeos fondos europeos en embrión

pero todavía rodeados de brumas no sabemos de cuánto dinero dispondremos ni qué proyectos desgraciadamente se verán beneficiados ni si se verán verdaderamente transformadores pero sí sabemos que la contrarreforma laboral o la indefinición del futuro de las pensiones y algunas cosas más pueden retrasar o dificultar la llegada de esos fondos a españa

fiarlo todo al maná de los fondos europeos no es lógico ni necesario porque la verdad es que su gobierno cuenta con fondos propios sin necesidad de esperar a los fondos europeos

porque cuentan con fondos suficientes también para absorber el impacto sobre la recaudación de cualquier caída de actividad o reforma fiscal que se acometiera a este respecto su plan c son los remanentes es verdad que no les gusta hablar de ello

menos conocido porque descubre las carencias de su gestión al fin y al cabo una cosa es que las administraciones públicas recauden para cubrir el gasto que realizan pero otra muy distinta y sin ningún sentido es que su gobierno genere y señor azpiazu ingentes excedentes no utilizados

esos remanentes sin duda estarían mucho mejor desde nuestro punto de vista en manos de los ciudadanos

la crisis provocada por el impacto económico y social de la covid diecinueve no ha servido para que este gobierno mejore en eficacia eficiencia o capacidad de gestión con las últimas cifras reconocidas por el gobierno no son nuestros números

los remanentes acumulados en los últimos años superan mil millónes

así lo contaba el señor consejero en un conocido foro público hace unas semanas y no hay motivo para dudar del dato en todo caso

habrá seguido creciendo tampoco encontramos disposición a aflorar todos esos remanentes remanentes que tienen un origen muy claro pese a que cada año se dispara el gasto corriente

la mitad el cincuenta por ciento de la inversión no se ejecuta así año tras año se ha generado esa ingente bolsa de remanentes y no es todo

a modo tío gilito hay que sumar los remanentes de otros entes y sociedades públicas y aquí la opacidad es todavía mayor si me lo permite pero algún dato conocemos de modo oficial por cierto subrayo oficial por el propio gobierno y es muy revelador por ejemplo solo lanbide lanbide fíjense

doscientos setenta y dos millónes de remanentes doscientos setenta y dos millónes han oído bien que crecen todos los años por tanto

otra cosa es que ustedes no quieran porque están cómodos acomodados diría yo les va bien así aunque a los ciudadanos al país no le vaya también porque

es vergonzoso que tanto comerciantes hosteleros autónomos

sigan al margen de las ayudas que llevan más de un año solicitando los remanentes debieron utilizarse en ese

y en paliar un impacto económico y social de primer orden sobre familias comerciantes hosteleros y tantas otras empresas de nuestro país ustedes no quieren emplear los remanentes para lo que son para mejorar la vida de los vascos

después de todo tienen mayoría un socio poco molesto mientras se pague la nómina a fin de mes y su prioridad no es revisar

a menudo pero que siguen ahí cada año en sus presupuestos y en la ejecución de los presupuestos ejecución por cierto que llevan muchos años sin remitir a la cámara

por ejemplo siguen ustedes siendo incapaces de contener

todos los años gastan en exceso sobre lo presupuestado y dejan sin ejecutar la inversión y claro

las restricciones legales que les impedirían esa transferencia de fondos de inversión a gasto corriente

y cumplir el presupuesto aprobado por esta propia cámara tampoco

les hemos propuesto un límite de doscientos pues bien no contentos con incrementar su número siguen incrementando los sueldos e insisto

la misma subida aplican al personal directivo de los entes y sociedades públicas y se niegan a prohibir como sucedía al menos hasta el dos mil seis

con ese mismo personal directivo en caso de extinción por sus contratos es decir se niegan a prohibir los contratos blindados de directivos

administración institucional y la verdad no creemos no creemos

por supuesto hay dinero siempre lo hay para los antojos políticos o los chiringuitos

a los sufridos contribuyentes vascos nos toca financiar euskaldunización en francia o pagar los ingresos

de una representación exterior hipertrofiada en dos mil veintidós sumaremos otro millón de euros se dice pronto otro millón de euros para tener presencia en parís su mitomanía nos sale carísima

se lo digo es también a la racionalización de nuestro extenso extenso y complejo

sus informes hablan de la posibilidad de ahorrar cuatrocientos millónes evitando

oportuno poner límite al pozo sin fondo de las pérdidas de euskal irrati telebista

algo así como setenta y cinco euros por habitante de euskadi y año o reconsiderar lanbide para tratar de superar

sí se han ocupado de sustituir en cambio el efectivo control de los fondos europeos por la información al parlamento porque lo que sigue brillado por su ausencia es la capacidad efectiva de la cámara

como otros años los mecanismos previstos para su incorporación y aplicación favorecen la opacidad y no creemos desde nuestro grupo partido popular y ciudadanos

la llegada de tales fondos como ven no faltan razones para pedir la devolución del presupuesto pero nuestro grupo pp ciudadanos considera que es posible hacer las cosas de otro modo

enmiendas parciales y al texto articulado del proyecto de ley

la reasignación de partidas y las prioridades que planteamos representan en la práctica un proyecto alternativo al que nos someta a consideración el gobierno un proyecto con siete ejes fundamentales desde nuestro punto de vista primer lugar

entre gobierno vasco diputaciones forales también con los ayuntamientos de nuestra tierra

esa reforma fiscal que debe reducir la presión tributaria sobre familias autónomos y empresas en primer lugar primer eje ya lo he venido diciendo aparte de ese acuerdo institucional debemos también disponer de un instrumento fundamental para ello que es el concierto

y podemos hacer más y con más facilidad de lo que hacen otros con menos recursos y competencias fiscales y ustedes

no lo están haciendo los vascos necesitamos afrontar

y salida de la crisis en las mejores condiciones queremos por tanto revisar el conjunto de las cargas fiscales y favorecer una mayor disponibilidad de recursos por parte de los ciudadanos en segundo lugar segundo eje incorporación a los presupuestos del dos mil veintidós

comentado anteriormente ese dinero está ahí y está para ser utilizado en beneficio de los vascos

derivada de la reforma fiscal propuesta garantizando por tanto el nivel de los servicios públicos también facilitaría la financiación de las partidas y planes que desarrollaré a continuación en esta tribuna

y a sectores enteros en nuestra tierra no tiene sentido proceder de otra manera

a la recuperación económica y del empleo y otro tanto deberían hacer entes y sociedades públicas en relación con sus propios remanentes creemos que se debe establecer un calendario y una fecha límite para aflorar también esos remanentes de hecho sería imprescindible comenzar por cuantificarlos

sería establecer un compromiso del gobierno en relación con la ejecución de los presupuestos por supuesto se debe poner coto al crecimiento del gasto corriente y para ello es necesario vetar por ley la transferencia de fondos presupuestados para gastos de inversión a gasto corriente

con mecanismos que garanticen una mayor ejecución de las inversiones presupuestarias es una muy vieja asignatura pendiente en la que el gobierno vasco necesita mejorar de nada sirve presupuestar como este año mil doscientos millónes de euros en inversiones

en su mayoría se quedan como todos sabemos de antemano en el papel y sin mayor traducción práctica sobre el terreno y por hablar ya de lo inaplazable hay que fijar un calendario definitivo

digo llegada efectiva y calendario definitivo porque lo del gobierno del señor sánchez es una tomadura de pelo pero también hay que contar con el compromiso de las instituciones vascas

que es lo único que hoy tenemos sobre la mesa otro tanto y solo depende de nosotros mismos

por ejemplo financiación firme y calendario definitivo también son fundamentales para contar de una vez con la línea cuatro y cinco del metro de bilbao

un compromiso por la racionalización y la modernización del sector público una complejidad institucional como

mejora permanente y por eso para comenzar como ya he dicho es necesario contención del gasto corriente puesta en práctica de los propios informes del gobierno

solapamientos competenciales o duplicidades administrativas y para continuar una buena poda

extenso entramado de entes organismos sociedades públicas que nos permita ganar en eficacia y eficiencia he comentado antes el caso de e i te be pero también el ivap lanbide son sumideros de recursos públicos

basta ver las audiencias o los índices de satisfacción de los usuarios en quinto lugar apoyo a las familias y modernización de las políticas sociales proponemos desde nuestro grupo pp ciudadanos incorporar este mismo año en este presupuesto

tras el impacto de la pandemia las familias precisan más que nunca programas de respaldo

son necesarias nuevas medidas en materia de conciliación de vida laboral y familiar y debemos prestar mayor atención a paliar la pobreza energética de muchos hogares

a vivienda en alquiler como es obvio ganar en eficacia y eficiencia en los servicios sociales

de modo que se garantice la ejecución de las ayudas y que sus beneficios sean quienes verdaderamente las precisen naturalmente no se puede bajar la guardia

insistimos en el refuerzo de la atención primaria y en la adquisición de material sanitario

en cualquier momento lo estamos viendo de nuevo estos días desgraciadamente podemos volver a encabezar estadísticas de incidencia de la covid diecinueve que no deseamos encabezar

y contar con fondos para la contratación y muy importante

sexto lugar hemos propuesto la creación de un fondo especial

dotado con seiscientos cincuenta millónes de euros se trataría de un fondo con cargo a los remanentes acumulados de ejercicios anteriores como antes he dicho

es decir en los ejercicios dos mil veintidós veintitrés y veinticuatro de este modo se lograría un primer efecto aportar un marco de estabilidad

en circunstancias que son y van a seguir siendo de notable incertidumbre creemos que es una necesidad ineludible

el objetivo del fondo es claro ayudar a superar la situación presente

afrontar mejor las incertidumbres futuras mejorar nuestra posición en suma

los destinatarios de todo ello serían tantos comercios como industrias afectadas por la crisis

que se trate de proyectos viables el fondo permitiría a quienes accedieran a él tanto superar algunas dificultades coyunturales

como efectuar nuevas inversiones y ganar tamaño o abordar

oportunidades de expansión e internacionalización y finalmente séptimo eje una apuesta decidida por la formación y la educación

para su dotación bastaría con aflorar parte de los remanentes existentes en algunos de los entes y sociedades públicas en algún caso insisto

el primer objetivo sería avanzar en la convergencia con europa

reforzando las partidas destinadas a la formación y a la investigación lógicamente un segundo objetivo sería el refuerzo del sistema educativo

cero tres años agilizar el proceso de modernización y digitalización de las redes pública y concertada en la enseñanza no universitaria actualizando además

y el tercer objetivo sería mejorar la capacitación del personal al servicio de las administraciones públicas y para ello debería incidirse tanto en la formación como en incentivos a la especialización son lo ven ustedes siete ejes

rutinarias conformistas lehendakari desde nuestro punto de vista ni el señor azpiazu ni el gobierno en su conjunto pueden comportarse como meros administradores su obligación

el presupuesto y el conjunto de los recursos públicos al servicio de los ciudadanos de la recuperación y también lógicamente cómo no del empleo en nuestra tierra y eso no se logra

y como siempre creemos que nuestra propuesta está sin duda mejor orientada que su proyecto o que lo que pueda resultar con el pacto con bildu más centrada en las personas en las necesidades de las familias o los autónomos

y por eso hemos hecho esa propuesta creemos que nuestras prioridades son también más claras que sus pactos más o menos expresos más o menos opacos

pero sobre todo la nuestra es una propuesta más cercana al modo de actuar de quienes están saliendo más rápido de la crisis a quienes lideran sus comunidades y ponen todo su saber al servicio de un futuro mejor para todos no han querido abordar en serio una negociación para hacer de los presupuestos ese instrumento útil para la recuperación y para construir ese futuro

seguir defendiendo una alternativa que ponga a todos los vascos

en el primer plano en nuestra vida política y en nuestra vida social en esta tierra por todo ello señorías

y ciudadanos solicitamos la devolución al gobierno del proyecto de ley de los presupuestos para el dos mil veintidós y pedimos también

el respaldo de la cámara para su reelaboración conforme a las líneas que acabo de defender en esta tribuna muchísimas gracias eskerrik asko

populares ciudadanos al igual que vox no ha presentado ni ha pedido una sola aclaración por escrito sobre los presupuestos y ahora se pueden entender tanto su enmienda como su discurso porque han conseguido transmitir que tenían claro desde antes de que el gobierno presentara sus presupuestos que esto no iba a con su grupo que ustedes

aunque aquí representan a la ciudadanía vasca que les vota y no a ayuso

de modo diferente a las presentadas en años anteriores pero con el mismo contenido y como novedad en estos presupuestos para dos mil veintidós está el proceso de negociación en el que esta vez no ha habido autoexclusión declarada pero sí autoexclusión efectiva

su propuesta porque sabían de antemano la imposibilidad con esos mimbres de acometer con visos de seriedad una negociación rigurosa

que euskadi es una de las comunidades autónomas con mayor ejecución presupuestaria de españa

en plena pandemia y con un noventa y seis coma tres por ciento en obligaciones reconocidas y con datos a mes de noviembre estamos en el ochenta y nueve por ciento del presupuesto ejecutado

diciendo que este prioriza la recaudación antes que el servicio a la ciudadanía cuando el concierto económico además de vertebrar a través de un pacto las relaciones tributarias y financieras entre el estado y el país vasco permite la financiación de las instituciones vascas y por lo tanto

no consideran estos presupuestos como falsos o falseados ahora dicen que las previsiones están desfasadas y creen haber descubierto la pólvora tenía que haber estado atento porque el consejero azpiazu ha dicho que se ha reconsiderado el cuadro macroeconómico

y por eso dice que son previsiones desfasadas hete aquí una novedad

se enredan como es habitual desde hace años con una fiscalidad de subida de impuestos que contradice la queja de otros grupos porque no se ha abordado todavía el debate fiscal que tenemos comprometido hablan ustedes de inejecución presupuestaria y critican ese gasto a manos llenas del gobierno

no le digo ya a su tabú el gobierno de pedro sánchez ni a los trabajadores sino ni siquiera reconocen el enorme esfuerzo de las empresas por concertar las medidas

y del empleo más rápido de lo previsto inicialmente y vuelven con la cantinela de que los presupuestos tienen los mismos lastres de años anteriores no no señor iturgaiz

desde que dejaron el gobierno de españa con una posición fijada de antemano

hablo de delegaciones de euskadi en el exterior que son instrumentos importantes para la puesta en marcha de la estrategia marco de internacionalización

y de la generación de empleo y de la triple transición que hay que abordar asesorando a los agentes económicos vascos en su proceso de internacionalización en cuanto a políticas familiares pues ustedes su prestación es un derecho y el presupuesto

con programas específicos dirigidos a la infancia y a la adolescencia con novedades en las líneas de ayudas a la conciliación para excedencia

para el cuidado de personas con dependencia o en situación de extrema gravedad sanitaria o las ayudas a la conciliación para la contratación de personas trabajadoras

otros elementos de apoyo a las familias previstos que aumentan el presupuesto son la descentralización del servicio de mediación familiar la extensión del programa de apoyo a familias monoparentales la equiparación de permisos en unidades convivenciales monoparentales

cuenta con el mayor presupuesto de todos los departamentos del gobierno vasco y supone un gasto sanitario per cápita de mil novecientos ochenta y cuatro euros para dos mil veintidós ciento uno euros más por persona respecto a este mismo año dos mil veintiuno y ese dinero es para reforzar el sistema vasco de salud la atención primaria

la atención sociosanitaria y la innovación y la investigación sanitarias y en materia de transporte ustedes saben o debieran saber que el gobierno vasco ha apostado por la interoperabilidad de los títulos de viaje existentes en euskadi en todos los medios de transporte público independientemente del territorio histórico

metro bilbao pues está prevista la licitación del proyecto constructivo en el ejercicio veintidós y para ello ets cuenta con una partida específica de inversión

están listos para su licitación pendientes de la confirmación de fondos europeos para su inicio inmediato esto lo hubieran sabido si hubieran preguntado al gobierno pero ya se lo contesto yo en fin del tav

y quedaron aprobados y claramente establecidos cuáles son los compromisos porque se aprobó la enmienda presentada por los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos y respecto a las ayudas a la industria y al comercio y a ese fondo que ustedes proponen el departamento de turismo comercio y consumo ya ha establecido un programa de ayudas al impulso al emprendizaje a la innovación

un programa de reactivación de mercados sostenibles y áreas comerciales urbanas y además nos parece un error que cometen ustedes al presentar ese fondo

exclusivamente porque se olvidan del resto de sectores productivos de la economía vasca como ha sido el turismo y la hostelería que también han padecido caídas en la actividad muy importantes y para los cuales se han destinado muchos millónes de euros

en una fase de resistencia y con ese fondo que ustedes proponen dónde quedan para el partido popular y ciudadanos esos sectores de hostelería y comercio ahora no importan para el partido popular estos sectores ya se han recuperado de la crisis

de importancia en euskadi pues para los socialistas vascos y para el gobierno vasco estos presupuestos contemplan la recuperación del comercio

del turismo y de la hostelería sectores que se han visto afectados por la crisis y que han recibido en esa fase de resistencia

para mantener como le decía la actividad económica y el empleo y para dos mil veintidós hay una capacidad económica prevista de gasto de más de cincuenta y dos millónes de euros en el departamento

importante contando con los fondos europeos que van a permitir una capacidad de gasto de setenta y nueve coma tres millónes de euros un cuarenta y seis por ciento de la capacidad de gasto

a inversiones el punto fuerte de estos presupuestos y una fase por tanto de reactivación y de relanzamiento de los sectores productivos en clave de inversión pública y se atreven a decir que la crisis derivada de la covid diecinueve no ha servido para que el gobierno mejore en eficacia eficiencia y capacidad de ejecución y decir eso

porque cómo y de dónde piensa el partido popular ciudadanos que salieron los fondos para hacer frente a la covid diecinueve para atender a los sectores como ese comercio turismo y la hostelería

de dónde salieron y cómo se hicieron efectivas las ayudas complementarias

de dónde salieron y cómo se aplicaron las líneas de créditos a pymes y autónomos de dónde salieron y cómo se aplicaron los programas destinados

los recursos a educación y a salud en la pandemia en qué realidad paralela han estado viviendo ustedes y viven ustedes

del partido popular ciudadanos en euskadi estos presupuestos son coherentes con el contenido del plan de ciencia tecnología e innovación en euskadi dos mil treinta con la estrategia marco de internacionalización euskadi basque country dos mil veinticinco con la estrategia vasca de empleo dos mil treinta

con el plan estratégico de transición energética y cambio climático dos mil veintiuno dos mil veinticuatro con el plan estratégico de economía circular y bioeconomía

con el plan interinstitucional de emprendimiento dos mil veintiuno dos mil veinticuatro con la estrategia energética de euskadi dos mil treinta

cuatro punto cero con la estrategia para la transformación digital de euskadi dos mil cincuenta y con el programa euskadi next fondos europeos y hace pocas semanas aprobábamos en el parlamento

para el periodo dos mil veinticuatro perdón dos mil veintiuno dos mil veinticuatro

la cantinela del dimensionamiento del sector público del incremento del gasto corriente del personal de libre designación etcétera etcétera que ya se repite y supone eso hacerse trampas en el solitario señor iturgaiz cuando está en tramitación el proyecto de ley del sector público vasco que establece entre otros asuntos

a ese dimensionamiento y transformación del sector público está proponiéndose la creación de una comisión interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector público que va a estudiar y formulará propuestas para tratar esas posibles ineficiencias

y a la retribución de los altos cargos cuando en comunidades autónomas gobernadas por el partido popular

pero para mí no tengo y hacen trampas también diciendo que el gasto corriente se incrementa cuando no es verdad el gasto corriente en estos presupuestos para dos mil veintidós en el capítulo dos

presupuesto de dos mil veintiuno del cero coma cinco por ciento y del uno coma cuatro por ciento en el capítulo de transferencias corrientes son incrementos de diecinueve millónes de euros y de cincuenta y tres millónes de euros en el capítulo dos y cuatro respecto a este año dos mil veintiuno

millónes de euros ese es el tremendo despropósito del gobierno con este planteamiento del incremento del gasto corriente de verdad

garantizar el bienestar y encarar el futuro como sociedad en una mejor posición y que todo eso se consigue con esos maravillosos ese milagro de los remanentes

una tomadura de pelo a qué cree el partido popular ciudadanos

de estos presupuestos para dos mil veintidós sino al relanzamiento económico de euskadi a qué cree el partido popular ciudadanos que se orientan los ejes principales de estos presupuestos el incremento del presupuesto en políticas públicas los más de mil seiscientos millónes de euros

los ocho de cada diez euros destinados al gasto social el mantenimiento del programa covid

en salud y en educación y la apuesta inequívoca de la perspectiva de género en estos presupuestos a qué cree el partido popular ciudadanos que se orientan estos presupuestos para dos mil veintidós sino a hacer valer el acuerdo de gobierno entre socialistas vascos y nacionalistas vascos cuyo objetivo es garantizar la salud de la ciudadanía la recuperación económica y el empleo sin dejar a nadie atrás y como novedad ahora nos hablan desde el partido popular ciudadanos de pobreza energética oiga miren la economía

el diario de sesiones noviembre dos mil catorce y por si fuera poco en votación repetida en diciembre mírense ustedes los papeles y cómo negaban la mayor

que con rajoy todo estaba muy bien miren la hemeroteca porque a pesar de eso y a pesar de que aquel día los socialistas no conseguimos sacar

en las semanas posteriores hicimos algo mucho más importante introducir por primera vez en los presupuestos

sufragar sus facturas energéticas y lo hicimos porque los socialistas vascos hemos sabido y sabemos negociar de frente y con sinceridad y desde entonces

en los presupuestos de euskadi y nos hablan ustedes de promocionar el alquiler de viviendas y nos hablan de eso a los socialistas vascos cuando se negaron en redondo por tierra mar y aire desde el gobierno de españa a la ley de vivienda de euskadi nos la recurrieron y cuando hoy por ley porque así lo dice el ordenamiento jurídico todo el dinero que se emplea en la construcción de vivienda es para vivienda en alquiler pero qué están inventando ustedes pero qué nos están contando de verdad

acordado por los agentes sociales en la mesa de diálogo social como si no contáramos hoy con una veintena de programas nuevos desde el departamento de trabajo y empleo

para avanzar en ese camino y son programas piloto sí por mucho que la señora garrido en las explicaciones que dio la vicelehendakari en comisión

pues sí revisen lo que dijeron los mayores expertos en el congreso de empleo

y lo que decía el comisario europeo que hay que impulsar programas nuevos distintos ensayar y corregir para mejorar y para acabar el asunto de los fondos europeos

y un notable esa es la nota que ha sacado del plan de recuperación español en bruselas el mismo plan

partido popular y ciudadanos y por el que se van a recibir unos fondos que según pablo casado e inés arrimadas

y que ustedes en euskadi repiten desoyendo lo que europa ha dicho unos fondos que van a tener control parlamentario con articulación presupuestaria y con objetivos específicos para euskadi tres de diciembre de dos mil veintiuno

españa ha avanzado lo suficiente en implementación de su plan nacional next generationeu por lo tanto será el primer país de la unión europea en recibir

lo que es bueno para españa es bueno para euskadi y lo bueno para euskadi es bueno para españa y por eso vamos a votar en contra de su enmienda a la totalidad para que no se devuelvan estos presupuestos

estamos en un gobierno y estamos en este parlamento no para cobrar un salario estamos para influir en política para ser útiles a la sociedad no como el partido popular ciudadanos

a los problemas de la ciudadanía sin darles una sola solución muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea berrojalbiz andrea zurea da hitza

con el momento socioeconómico requerían de su responsabilidad señor iturgaiz pero han vuelto a desperdiciar la ocasión desde aquí queremos aplaudir el esfuerzo del gobierno vasco y también de eh bildu en esta negociación esfuerzo con resultados positivos pero señor iturgaiz su

ha sido nula y su enmienda alejada del realismo y la seriedad requerida desde el primer encuentro

no es indicativo de voluntad de acuerdo más bien lo contrario era la pista de aterrizaje para lo que vino después la recepción de un documento de trabajo de brocha gorda una propuesta abstracta generalista ideologizada y que hacía imposible un acercamiento no lo perseguían pero al menos pues bueno no hicieron perder mucho tiempo al equipo negociador

parece que les sigue pesando lo que ocurrió hace tres años y medio en madrid porque desde entonces señor iturgaiz se han mantenido en una posición frentista en este parlamento y de verdad

realistas y comprometidas con las urgencias y retos de este país no se han parado a pensar en el beneficio que reportaría al conjunto de la sociedad

dicen que hay unas previsiones claramente desfasadas falso las previsiones son razonables

la prudencia y las cifras están bien encajadas problema ninguno señor iturgaiz y en los últimos años así ha sido no se ha dado no se ha dado sobre

y para este dos mil veintidós tampoco y le voy a ofrecer dos datos el incremento que se plantea

de las previsiones del incremento del pib nominal

y que además tal y como hemos escuchado solo algunos parece ser al consejero esta mañana que se espera del nueve coma tres por ciento ese el primer dato

la evolución de la recaudación que el último dato es a octubre del dos mil veintiuno quince coma cinco por ciento de incremento respecto del dos mil veinte que es superior

dos datos claros que hacen que

no quiere decir que el departamento no esté atento a lo que pasa en nuestro entorno como bien nos ha mostrado hoy el consejero

con una revisión a la baja de las cifras de pib real y nominal para dos mil veintiuno

pero eso no va a tener ningún efecto negativo en estos presupuestos los ingresos cubrirán los gastos y se podrá gastar sin mayor dificultad porque como he indicado anteriormente lo que marca estos ingresos

segundo argumento donde ya aquí han sacado toda la artillería y donde ya encuentra su zona de confort donde ya se crecen en nuestro acuerdo con euskal herria bildu nos acusan de bloquearles de imponer el credo nacionalista

plural y moderno y sí señor iturgaiz

y como nacionalistas vascos trabajaremos por articular políticamente los territorios vascos somos humanistas abiertos al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en el beneficio del ser humano eta euskara

únicamente una administración que recorra junto a la sociedad el camino del bilingüismo

y en este camino señor iturgaiz y con estos valores

y segundo que ni el partido nacionalista vasco ni este gobierno ni si se me permite el partido socialista al pactar con bildu

lo único que demuestra este acuerdo es la capacidad de este gobierno y del lehendakari de llegar a acuerdos

también con podemos y ahora con bildu y es lo que evidencia exactamente eso nuestra capacidad de tejer alianzas con diferentes no creo que ustedes

y ponían además en valor los acuerdos municipales recuerda usted lo que decía el señor maroto cuando era alcalde de gasteiz se lo voy a recordar

no hay ningún inconveniente para el acuerdo porque el acuerdo es bueno maldita hemeroteca eh estará diciendo

me podría explicar señor iturgaiz de qué depende que el pacto con bildu sea o no bueno de la necesidad del momento

tenga claro que para nosotros unos y otros están en el tablero de juego están en el sistema

creemos en la política como valor para transformar la sociedad y la sociedad se transforma con acuerdos

tenemos un lehendakari y un gobierno que no está en el yo gano tu pierdes sino que están en la concordia en forjar espacios comunes para que un pueblo para que el pueblo vasco avance

continuando con su enmienda lo que usted califica de plan b y lo que yo califico de prudencia seriedad y rigor en la gestión de los recursos públicos los fondos europeos

critican la ausencia de control parlamentario sobre los fondos europeos y su opacidad bien sabe usted que los fondos vinculados

no pueden financiar actuaciones ya contempladas en el presupuesto ordinario ni gasto corriente criterio de adicionalidad y es lo que usted ha hecho es que además salvo que usted me indique que pueden cuantificar el importe de los fondos

en estos momentos lo contrario sería una imprudencia por tanto

imputable a este gobierno que además en un ejercicio de transparencia se ha autoimpuesto comparecer trimestralmente ante este parlamento para dar cuenta de las novedades en torno a los fondos europeos

porque si es que la tienen no nos la han enseñado porque hoy estoy segura de que de haber querido ustedes

no siendo ciertamente su propuesta su proposición se basa en una propuesta fiscal bajar impuestos reducir gasto corriente por cierto flaco favor le hacen a osakidetza porque sin este presupuesto osakidetza es gasto corriente utilizar el excesivo remanente de tesorería consecuencia de las inejecuciones

se situó en el año pasado en el noventa y ocho por ciento y en inversiones en un ochenta y nueve por ciento eso sí y sin sonrojarnos y con total franqueza

y así lo planteó el señor consejero el reto de la ejecución presupuestaria también crear un fondo para pymes y familias y eliminar partidas destinadas a e i te be

compraría pero que nosotros rotundamente no señor iturgaiz porque menos impuestos

deterioro de los servicios públicos es menos prestaciones y es menos bienestar nuestro modelo persigue fortalecer lo público garantizar la igualdad de oportunidades y construir una sociedad solidaria y justa y para ello un sistema tributario equitativo progresivo y suficiente

de riesgo unilateral que exige mucha responsabilidad en la gestión de los recursos públicos

equitativo progresivo y suficiente sustenta este presupuesto garantizando y reforzando el sistema público de salud educación protección social e inversión

a unos pocos ponga en riesgo todo lo demás nosotras no y es por ello que no compartimos con ustedes su lema de low taxes economy

concluye que los argumentos económicos para mantener bajos los impuestos a las rentas altas son débiles aumentando la desigualdad de ingresos con todos los problemas que ello conlleva

años este gobierno combinando el atractivo económico tributario impulsando la internacionalización

para así retener y atraer el valor añadido políticas que se traducen en cifras en este presupuesto setecientos setenta y siete millónes de euros para el departamento de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente que crece a un dieciocho coma ocho por ciento para acelerar la reactivación económica generadora de empleo

sociosanitaria como oportunidad para fortalecer la competitividad para ello este presupuesto esta línea en torno a cuatro

la primera plan de ayudas a pymes dos mil veintidós dotado con quinientos setenta y nueve millónes de euros con un crecimiento de treinta y dos

para la economía circular ayudas al primer sector segunda línea de acción el plan de inversiones y acciones para la transición energética y climática trescientos cuatro millónes de euros

energético climática y sociosanitaria y ahí por ejemplo ciento veintiséis millónes para las redes de parques tecnológicos veintiuno millónes para la dirección de proyectos estratégicos diecinueve coma cinco

y cuarta actuaciones en municipios y comarcas y especial cuidado de zonas desfavorecidas hasta ciento ochenta millónes de euros al que se le suman otros veinte del programa industrial indartu para ayudar a la industria en zonas desfavorecidas y municipios con mayor tasa de desempleo

y doce para los venideros innovación que también se impulsa desde la salud y la educación ejemplos tenemos recientes cuatro coma dos millónes de euros para los centros concertados de fp

o los tres coma nueve de las tres universidades vascas para financiar programas digitalización salud y universidades más educación

en euskadi y en el mundo desde el punto de vista energético y climático

aspectos que este presupuesto sigue cuidando de manera intensiva y prioritaria en línea con lo realizado en los últimos años y que lo enmarca con el nuevo plan

que nace con la voluntad de situar a euskadi en el lugar en el que queremos estar un país

y del saber hacer un país que retiene talento donde como ejemplo bilbao se sitúa en cuarta posición a nivel mundial en el ranking elaborado por la prestigiosa escuela de negocios internacional insead y también el reconocimiento de la revista financial times

pequeño en europa que ha sabido reinventarse a través de la innovación

y los elementos para explicar el éxito son la visión los objetivos el autogobierno el trabajo por el bien común

y la colaboración público privada una fórmula de éxito para lo que tendremos que seguir trabajando y para lo que este presupuesto ofrece

ha sacado la metralleta de varios temas y entonces le voy a ir intentando contestar a algunos de ellos

yo tengo los pies en el suelo y yo escucho yo paseo y escucho a autónomos a comerciantes a hosteleros a industriales etcétera etcétera y no se haga líos

el turismo los autónomos son nuestros referentes todos los días señora corcuera también en nuestras enmiendas

quienes han defraudado todas las expectativas absolutamente todas las expectativas

mire usted qué obsesión tiene usted de que preguntemos pero igual es que usted no se ha enterado o no se da cuenta o no está atenta en mi vecindad de las preguntas que hacemos

si yo hemos hecho muchas preguntas al consejero al señor azpiazu

yo mismo al lehendakari en los plenos de control sobre los temas que usted me decía si es que la señora laura garrido porque en el tema de los remanentes que usted ha sacado anteriormente y hablábamos del tema de lanbide que conocen ustedes por cierto los socialistas muy bien

del trece de diciembre nos dicen que el remanente de tesorería de lanbide a treinta y uno diciembre del dos mil veinte

y el remanente de tesorería de lanbide a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve era de doscientos treinta y seis millónes

si hay remanente pero ustedes quieren ocultar que hay

a las instituciones y hemos advertido muchas veces también señora corcuera

estaba desfasado luego aparecen estas noticias la economía vasca se enfría fuerza al gobierno a rebajar su previsión como usted ve y como usted ha leído se dice subida fiscal encubierta claro y cuando esto lo dicen los medios de comunicación y lo décimos desde la oposición

atacan a los que venimos aquí a traer a traer la verdad verdades como puños sin duda alguna en todo caso señora corcuera estoy de acuerdo con la crítica que le ha hecho

el gobierno vasco el señor azpiazu al señor sánchez por el tema de los fondos de la gestión de los fondos europeos se acordará usted

este gobierno es incapaz de ejecutar las inversiones en los últimos años se lo he dicho anteriormente se lo vuelvo a repetir no ha llegado a cincuenta por ciento

al cincuenta por ciento y usted que habla insisto otra vez de tanto remanentes y tantos planteamientos mire usted si estos presupuestos señora corcuera son tan buenos como

bajen los impuestos como he empezado a decir porque al final si ustedes no bajan los impuestos

a las familias estamos haciendo un plus un plus de desequilibrio

y sí se pueden bajar los impuestos señora corcuera como lo ha visto en la comunidad de madrid ya que la ha citado en varias ocasiones se pueden bajar los impuestos sin duda alguna y no perder gastos y gestión si se hace una buena gestión

una ayuso en la comunidad autónoma vasca eso es así eso es así en el dos mil catorce el incremento de precios de la energía señora corcuera se acuerda usted

era del cinco por ciento se acuerda su jefe de filas o su presidente que es el mío también el de españa que es el señor sánchez cómo pedía la dimisión

por el incremento del cinco por ciento hoy batimos records todos los días con precios que triplican la de hace un año la de hace un año señora corcuera

pobreza energética a todas las familias lógicamente y eso es lo que ustedes

no reconocen que la política suya energética está endeudando empobreciendo a las familias de este país

yo no sé si estuvo usted en la asamblea de su partido hace poco me dice que sí yo no sé si ahí se enteró

epítetos la historia el curriculum vitae que yo no lo pongo en duda además lo

pero le ha faltado decir algunas cosas más que usted como ha dicho que estuvo en aquella asamblea usted escuchó que ahora el pnv es

y a favor del derecho de autodeterminación así así lo dijeron ustedes

verde por fuera rojo por dentro a favor de ese derecho de autodeterminación pero en su historia

nacionalista vasco también hay cosas que usted no las ha recordado

en la cámara europea han pasado de ser democristianos

por cierto que les echaron en la asamblea de santiago de chile pasaron sí sí bueno ustedes dicen eso es de chulería a decir nos fuimos

les echaron luego se pasaron a ser verdes verdes

luego estaban muy incómodos y entonces se fueron a los liberales allí con algunos partidos políticos que podíamos comentar dice pero ahora

a ser los verdes otra vez ya que vuelven a decirnos que son verdes y de izquierda

en europa a esa izquierda donde están sentados los dirigentes de podemos en los escaños de bruselas y

tiene uno la razón o más razón ustedes han jugado

porque ni están en el gobierno de españa ni se lo dejaba a pablo casado así que no les quedaba otra

no tenían el no preestablecido que tenían que escenificar esa decisión

interesados en una negociación y justificar con los mismos argumentos de siempre y con propuestas

unos presupuestos que tuvieran el contenido que tuvieran contaban ya con su rechazo de antemano y yo no quiero ser malpensada pero esto de que critiquen ustedes el concierto económico diciendo que no sirve a la ciudadanía a mí me parece muy peligroso a mí me parece muy peligroso y además está en contra de lo que ustedes estaban diciendo desde el partido popular igual es porque tienen una alianza

esas incertidumbres y esas dudas vamos a ver yo le he dicho que no estaba atento porque el consejero ha dicho que el cuadro macroeconómico cambiaba lo ha dicho hoy y no ha anotado y claro como no ha anotado pues no lo ha podido

en un cuadro macroeconómico que no responde a las previsiones que se lo ha dicho el consejero que no se lo he dicho yo

y rutinarias las cuentas claro porque hay unas líneas estratégicas que están ya prediseñadas

y estos presupuestos lo que hacen es avalar esas líneas estratégicas cómo lo hacen planteando en esta ocasión

para el relanzamiento económico de euskadi así de simple eh así de simple pero claro no queremos entender porque no nos interesa entender le decía

es que el sector productivo vasco el tejido productivo y económico vasco

no pueden ustedes basarse solamente en dos elementos económicos en euskadi eso es lo que le estoy echando en cara y a mí no me venga con estas historias de que no no ustedes no han hecho nada están tienen vamos al comercio al turismo y a la hostelería enfrente de ustedes

a pulso eh a pulso con realismo eh ciento veintiséis millónes de euros eh ciento veintiséis millónes de euros que se dice fácil no tanto venir aquí a la tribuna a lanzar cuatro cositas al aire cuatro propuestas y quedar como diciendo a conciencia tranquila no no no aquí hay que venir con propuestas

y estos presupuestos también eran para arrimar el hombro porque el partido popular se hubiera sentido cómodo en estos presupuestos pero han venido cuestiones externas

a lo que es euskadi y no les ha quedado a ustedes más remedio que decir que no

pero vamos a ver que hemos pactado cuestiones de reformas fiscales

no es imposible es que no se quiere y han perdido una oportunidad y tenían pueden decir bien claro que no hay altura de miras en el partido popular ciudadanos

a la salida de la crisis de nuestro tejido económico es decir no a la cohesión social necesaria en euskadi es decir no a la salida de la crisis sanitaria económica y social que requerimos es decir no a tener procesos transformadores en los retos de futuro que tenemos aquí delante y eso eso lo han decidido ustedes

cuando muchas veces aquí se aprueban enmiendas que ya nos solemos echar unas risas a que sí qué socios tenemos no es que como está señalando ahí yo lo que le quiero decir

es que hoy han perdido una oportunidad más de tener altura de miras de arrimar el hombro no lo han hecho y no han querido hacerlo nosotros los socialistas vascos estamos orgullosos de este gobierno y de los partidos que lo sustentan porque han hecho posible y realidad un compromiso de país consiguiendo consensos amplios

en el diálogo social y en el diálogo político en este parlamento por lo tanto rechazaremos votaremos no a su enmienda a la totalidad muchas gracias eskerrik asko

señor iturgaiz nuestro valor es la predecibilidad somos previsibles

estamos apegados a la sociedad vasca que es a quien nos debemos y nos vamos adaptando no somos unos veletas como son ustedes

intenta o se basa en etiquetas es porque no tiene un proyecto porque no tiene contenido siempre intentan

no voy a etiquetar a este partido porque lo que nos importan son las personas y además con su discurso bueno y con un mix de todos los discursos

me siento como si fuera una bolchevique radical al lado de los de podemos una neoliberal pero de pata negra

y es lo que opina la gente es que somos la solución a sus problemas eso es el partido nacionalista vasco sin etiquetar

para la nueva marcha y me voy a centrar un poco en temas más presupuestarios que es a lo que hoy estamos

y para generar un ecosistema atractivo también deben estar ahí ustedes hay muchos factores uno el político el que estamos diciendo otros la productividad

las políticas públicas del gobierno la fiscalidad las infraestructuras como el tav y por supuesto

un porcentaje muy potente que nos habla de justicia social cohesión solidaridad

un elemento que está en su mano con el que puede contribuir a generar un ecosistema atractivo sin etiquetas sin distinciones políticas sino de aunar es aportar estabilidad política señor iturgaiz una gente que construye

le aseguro que la sociedad vasca valora más esa actitud que la contraria y la confrontación a la que estamos últimamente acostumbrados y remando en la misma dirección

quien gana es euskadi es el momento de crear consensos para euskadi más fuerte más competitiva

y etiquetar donde quiera el objetivo de país que tenemos es ambicioso situar a euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en dos mil treinta

le recuerdo que en el mes de julio la comisión europea publicó el informe con las clasificaciones de innovación regional y euskadi está entre las regiones europeas de alta innovación

invirtiendo en futuro en el futuro de esta sociedad y en buena medida esa inversión es posible por el remanente que ustedes tanto critican

los datos el remanente no son mil millónes de euros son setecientos cuarenta y cinco con el último dato disponible de ejecución

es la tesorería que se estima necesaria para hacer frente a cualquier contingencia como ocurrió en dos mil veinte con la pandemia el remanente hizo posible hacer frente a la crisis sanitaria y económica destinando nada más y nada menos

que las cuentas y la sociedad avalan una política clara que prioriza lo social que prioriza a las personas y como dato

el reto demográfico el modelo educativo y las familias que también usted cita me quedaré con el gran reto que todas las instituciones tienen entre manos el demográfico la sociedad vasca

y gestionar el ciclo de relevo generacional tan amplio en la pirámide demográfica y ahí las nuevas partidas en materia de reto demográfico en la dirección de juventud

más datos respecto a las ayudas a familias que entiendo ustedes en su crítica se ciñen a las ayudas a las familias en una definición ciertamente particular que se contempla en el departamento de igualdad justicia y políticas sociales que suma nada más y nada menos

y en todo caso también a determinadas becas del departamento de educación partidas que mínimo son cincuenta y ocho millónes nada más y nada menos y así y todo pues pide más pero le diré porque ustedes obvian la existencia de otra serie de partidas con impacto directo en las familias como la rgi y la prestación complementaria de vivienda que suman

al derecho subjetivo de vivienda o las destinadas para el quinto plan de apoyo a las familias

justificativa de su posición negativa y poco constructiva cuando realmente lo que piensan es

el pasado diez de junio que los presupuestos vascos fortalecen los servicios públicos literal eta hor ados zuekin baina ondo legoke hona etortzea zuen kontraesanak digerituta y por último nuestra gran diferencia

nunca nos encontraremos señor iturgaiz la reducción y el replanteamiento del euskera

mire sus enmiendas parciales y de ciertas entidades que ustedes plantean van en contra de nuestra razón de ser las delegaciones del gobierno vasco tienen un objetivo claro en la internacionalización y en la acción exterior de euskadi dentro de la estrategia como bien sabe

con unos objetivos de acción exterior distintos al gobierno de españa españa que ha repetido usted en numerosas ocasiones en su intervención

que califica estas delegaciones o a la spri de caprichos políticos así lo dice en su enmienda a la totalidad de caprichos políticos cuando sirven de nexo cultural y económico son para detectar oportunidades además de asesorar a agentes vascos en sus procesos de internacionalización y ahí se sitúa esa nueva oportunidad con la delegación en parís un país con estrechos lazos en diversos ámbitos que justifican su apertura eta amaitzeko eta zure baimenarekin legebiltzarburu andrea

y el mismo argumento me sirve para e i te be no sigan mezclando euskera y política por favor y trabajen por sumar

es la situación actual en la que se nos propone aprobar unos presupuestos que consideramos que son timoratos y escasos

lo cierto es que la política presupuestaria del gobierno sigue estando determinada por una ideología imperante en la última década y es

es un dogma que es autodestructivo que ha recorrido europa y que en nuestro espacio político trabajamos para desterrar definitivamente con esta perspectiva hemos acudido a las reuniones de negociación presupuestaria y con voluntad además de llegar a acuerdos

en la mejora del bienestar de la ciudadanía y la respuesta ha sido que no el consejero azpiazu advirtió que tenía disposición a alcanzar acuerdos en torno a las cuentas con la oposición siempre que se tratara de propuestas realistas y viables

pensamos que tomaba como tales simplemente aquellas que encajasen tal cual perfectamente en su proyecto que consideramos

muy lejos por cierto de las aspiraciones y de las necesidades de la ciudadanía vasca de las trabajadoras y de los trabajadores de este país se nos pedía

ni lo necesario a cambio de nada a nosotras

era de rigor reforzar la enseñanza pública era de rigor

de sanitarios de refuerzo en la pandemia ya perdidas era de rigor arbitrar soluciones para la escalada

la hegemonía del oligopolio eléctrico pero todas estas propuestas han sido rechazadas estos días se ha vuelto a decretar la cancelación de las intervenciones el aplazamiento de tratamientos y las consultas

me pregunto yo hasta cuándo cuántos de estos tratamientos en estos dos últimos años han llegado tarde cuántas personas están en su casa cuantos profesionales sanitarios están en estos momentos sin poder dar abasto para este gobierno parece resultar ser

y yo creo que ha quedado patente que no solo no es irreal sino que era y es necesario y también urgente en estos momentos el virus está marcando la tasa de contagio más alta de toda la pandemia a diez días de navidad novecientos treinta y siete de incidencia es un registro que nunca se ha visto

de la situación hospitalaria de verdad considera que no

sanitarios y sanitarias de refuerzo que es irreal que es una propuesta irreal la que teníamos

aurrekontuetan dauden gizarteratzeko tresna guztietan el resto de los servicios públicos la educación tampoco se ha recuperado de más de una década de su inversión pública y de

la capacidad de los servicios y de los bienes públicos este presupuesto además también cede la iniciativa para la transición ecológica paradójicamente privado en particular además al sector energético y eléctrico que son quienes en principio los causantes de la crisis climática este es el segundo ejercicio presupuestario en esta legislatura que nos traen a esta cámara y que no ataja ninguna de estas

pero que tampoco cimenta los pilares de las transformaciones estructurales que este país tiene que acometer para poder afrontar un futuro incierto con optimismo y con un proyecto de país sólido testuinguru honetan

milioi euroraino según su propio cuadro macroeconómico se espera un incremento del gasto final de las administraciones públicas del uno coma nueve por ciento para el año dos mil veintidós este incremento es el que cabría esperar en cualquier año normal de crecimiento

un año bueno pero en este contexto de crisis económica equivale en realidad este equivale a una retirada consideramos prematura de los estímulos

buscando empleo no es el momento de reducir el déficit sino de redoblar la apuesta por la sólida recuperación la ley de presupuestos vascos para este ejercicio dos mil veintidós debería ser la herramienta fundamental para la consecución de los fines públicos que en este contexto podrían sintetizarse en dos grandes bloques por una parte el blindaje y la expansión de los servicios públicos

segundo el apuntalamiento y la planificación de una recuperación económica que se ajusta socialmente y sostenible también desde el punto de vista medioambiental

no está a la altura de este momento histórico no podemos obviar la inquietud que nos causa

el anterior ya ha quedado superado se ha reconocido por los hechos una nueva oleada de la pandemia augura además nuevas restricciones y dificultades para múltiples sectores económicos se anunciaba un crecimiento económico en dos mil veintiuno del seis coma siete por ciento y del cinco coma siete por ciento

de responsabilidad fiscal ya prevé un comportamiento que es menos favorable del

del cuatro coma cinco por ciento lo cual teniendo en cuenta que se está comparando con el año dos mil veinte que fue catastrófico

ciertamente deplorable somos escépticos además

dos mil veintidós de hecho las estimaciones de crecimiento económico no dejan de menguar

que ahora lo deja en el cinco coma dos por ciento para el dos mil veintidós inferior al cinco coma cuatro al seis coma cuatro perdón que estaba previsto

exigido por las autoridades europeas ha desactivado la recuperación y nos ha instalado en una senda de crecimiento que es inferior de forma

a pesar de que los problemas ligados al mercado del trabajo son la principal preocupación de la ciudadanía vasca nos encontramos con unos presupuestos en los que el gobierno vasco no asume responsabilidad en la eliminación del desempleo el objetivo declarado es que la tasa de desempleo el próximo ejercicio sea del nueve coma cinco por ciento claro

cuadro macroeconómico nos parece que esto es una tasa

una noción recogida en la constitución es un gobierno consideramos poco ambicioso en materia laboral y esto constituye de facto

a los vaivenes de un mercado laboral que es endeble la precariedad

la constante necesidad de formación de una población sujeta a los caprichos del mercado son elementos que despojan a la población de su derecho a vivir y a trabajar en euskadi de establecer en este país en euskadi

de un mercado laboral que ya está muy precarizado a pesar de que en los presupuestos generales del estado español se admita una tasa de reposición del ciento diez por ciento

en determinadas funciones como son la educación o la salud

la relación de puestos de trabajo aquí apenas contempla variaciones

con carácter general la modificación de las plantillas presupuestarias mediante la creación de nuevas dotaciones de personal requerirá la consiguiente amortización de las dotaciones necesarias de manera que no representen superior coste anual

parece que este gobierno no quiere entender que sin empleo público de calidad y suficiente puede haber servicios públicos suficientes y de calidad si hablamos de fiscalidad otro de los problemas irresueltos largamente irresueltos en este país la fiscalidad en euskadi dista mucho de ser redistributiva

sobre los hogares de las personas trabajadoras las retenciones sobre las rentas de trabajo y las actividades económicas supondrán según la previsión de ingresos incorporada al proyecto de presupuestos el treinta y seis por ciento de estos

que es un impuesto que por su naturaleza indirecta recae

supondrá el veinticinco por ciento de la recaudación sin embargo las previsiones del impuesto sobre sociedades del impuesto sobre el patrimonio

y las ganancias patrimoniales representarán menos del siete por ciento del uno por ciento y del dos por ciento de la recaudación total respectivamente creemos que tenemos y los datos así lo corroboran un sistema fiscal que es profundamente clasista y regresivo y que

y un amplio surtido de incentivos para el ahorro y la configuración de carteras recuerda cada vez más a un sistema tributario más propio

impuestos la desigualdad creciente de nuestra sociedad reclama

urgente no solo por la necesidad de mayor equidad también también porque la desigualdad es un lastre para la recuperación económica

guretzat ez da nahikoa como he dicho la insuficiente inversión pública se traduce en menos dinero para cuestiones concretas que afectan a la población de manera directa una de ellas y fundamental en estos momentos es la sanidad

se debe evitar la provisión de servicios por debajo de los estándares de calidad porque ello repercute negativamente en la seguridad de los usuarios

por eso este gobierno debería haber incrementado el presupuesto destinado a la financiación sanitaria para ir en consonancia con la media de la unión europea

euskadi está entre las comunidades autónomas que menos invierten en salud pública en términos relativos de producto interior bruto la comisión europea

la situación de los sistemas sanitarios de la unión europea señala que el estado español destinó en dos mil diecisiete el ocho coma nueve por ciento de su pib a sanidad mientras que la media

invertidos bien pues en euskadi es el cinco coma dos por ciento del pib la inversión crónica

frente a una media europea de cinco por mil habitantes

tenemos también una de las ratios más bajas de camas uci según el ministerio de sanidad diez coma

de doce coma nueve en conclusión y para ir terminando estos presupuestos creemos que representan otra oportunidad perdida

consolidar una recuperación económica sino sobre todo para asegurar que esta sea inclusiva y que sea justa

con gestos testimoniales a la lucha contra el cambio climático pero que sigue además confiando en que el problema se arregle solo con pequeños incentivos de mercado son unos presupuestos con mucha palabrería

en cuestión de impacto de género son unos presupuestos que han renunciado a extraer aprendizajes de la crisis sanitaria

y sin precedentes pero parafraseando a y a lupo parole parole
lo que están haciendo es lo mismo de siempre eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea

egun on eguerdi on por resumir a mi compañera y portavoz

señor azpiazu los presupuestos del gobierno vasco para el año dos mil veintidós en nuestra opinión no son garantía de una distribución justa de la riqueza

ni de los recursos públicos para asegurar unas condiciones de vida dignas a toda la población ni para garantizar la necesaria igualdad y cohesión

a estos presupuestos desde nuestra posición de izquierda y desde luego saber el gobierno cuenta con una mayoría absoluta para sacarlos adelante

a plantear la alternativa política en forma de enmienda a la totalidad vamos a rechazar este año los presupuestos también en una ocasión en la que ha sido

a los mismos a cambio de modificaciones en partidas que no suponen ni siquiera el uno por ciento de los mismos y sobre todo que no suponen ningún tipo de cambio

curioso sobre todo después de escuchar en mi caso desde la barrera las duras críticas que eh bildu en su momento hizo a mis compañeras y compañeros de podemos por un acuerdo presupuestario que yo diría de

defenderemos por lo tanto hoy una alternativa al modelo del gobierno vasco en forma de enmienda a la totalidad y en consecuencia votaremos por la devolución de los presupuestos

conservan la misma lógica que en años anteriores un trasvase importante potente de dinero público al sector privado que venimos rechazando año tras año

de recorte a prestaciones sociales de quienes más lo necesitan y que tanto hemos criticado y nos han escuchado ustedes también

a través por ejemplo de una disposición adicional que nunca debió existir estos presupuestos

para el sector privado una parte del cual en este país vive exclusivamente de esos servicios públicos y recursos públicos y a costa de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores mientras a su vez mantenemos la mayor tasa de temporalidad en el empleo público de todo el estado es un modelo que sigue mimando en nuestra opinión

a las necesidades de la clase trabajadora a través de distintos programas y también a través de ese modelo

de los empleos por eso planteamos una alternativa hoy en este debate la cuestión era plantear una alternativa a unos presupuestos después de no haber llegado a un acuerdo sobre los mismos la alternativa que proponemos plantea

de los servicios externalizados y sobre todo dotar a la comunidad autónoma de un potente sector público para evitar entre otras muchas cosas pero aterrizando a lo más

que está agotado y con sobre demanda de trabajo

ahora que en nuestra opinión esta se ve amenazada por una reforma que si no cambian las cosas y lo vemos con mucha preocupación puede acabar reforzando el modelo educativo que tenemos con mayor presencia de centros privados financiados con recursos públicos de todo el estado y diría yo que de toda europa en detrimento de lo público

en desempleo con la riqueza que se genera en este país con la riqueza que se genera en euskadi y planteamos una alternativa

el bancario y desde luego en todo lo relacionado con los servicios esenciales para las personas y desde luego tampoco renunciamos a la más que necesaria reforma fiscal para que esta sea una efectiva herramienta de redistribución de la riqueza pero es verdad que nosotros creo que hemos hecho un esfuerzo este año

esta cuestión de la reforma fiscal en la negociación presupuestaria ante un gobierno que seguía o sigue negándose a negociar con elkarrekin podemos izquierda unida en el ámbito fiscal dentro del marco presupuestario cuando sí lo hizo con el partido popular en su momento yo

sin embargo creo que ese esfuerzo no ha sido suficiente porque el gobierno

solamente está dispuesto a negociar partidas concretas y por eso nosotros tenemos

no estuvo dispuesto a modificar un ápice sus políticas cuando necesitaba los votos o necesitaba votos en la oposición porque no tenía mayoría absoluta pues menos estará dispuesto y menos está dispuesto a hacerlo ahora que cuenta con esa mayoría absoluta por eso como decía tenemos más razones que nunca para plantear esta enmienda a la totalidad y votar devolución de los presupuestos de lo que yo llamaría la mal denominada colaboración público privada que creo que lo que esconde detrás son políticas conservadoras que establecen

la recuperación económica y social de euskadi y se debate si los grupos parlamentarios sabemos leer y entender la sociedad en la que vivimos y el parlamento en el que tenemos representación y los socialistas hemos sabido hacerlo a lo largo de ciento treinta y cinco años de nuestra historia hemos sabido entender

y para esta legislatura adquirimos un compromiso nítido con la ciudadanía que todos y cada uno de los votos que tuviéramos los íbamos a destinar a la estabilidad a garantizar la salud a la recuperación económica y social de euskadi y a no dejar a nadie atrás

con una hoja de ruta clara y que íbamos a acordar igualmente sin complejos ni vetos la ciudadanía vasca es la que nos dio la fuerza suficiente para hacer posible este gobierno y a continuación dijimos que a pesar de la mayoría absoluta íbamos a mantener esa mano tendida y sincera a quienes en esta cámara quisieran participar de este momento inédito que requiere de respuestas excepcionales una situación inédita que no puede arrastrarnos

a acomodarnos en nuestros escaños tanto de gobierno como de oposición y si la pandemia nos dio en su momento inicial una lección de humildad a todos y a todas en su evolución en sus sucesivas olas nos ha obligado a un esfuerzo de colaboración por encima de las querencias de cada cual y mirando el bien común

distintas fuera de todo cálculo electoral y político hoy los socialistas vascos al rechazar las enmiendas a la totalidad estamos ratificando ese compromiso que adquirimos con la ciudadanía en las últimas elecciones hacer que sus votos sean útiles que la acción del gobierno esté centrada en el rescate de quienes más están sufriendo

una situación extraña para todos y todas y también en empujar desde abajo una profunda transformación de nuestro país elkarrekin podemos izquierda unida presenta una enmienda a la totalidad tras un proceso de negociación que comenzó con una propuesta por su parte valorada en quinientos millónes de euros sin fijar

y que culminó sin éxito porque pactar no es renunciar pactar es encontrar puntos en común reconociendo las fuerzas propias y reconociendo la pluralidad es lo que venimos haciendo los socialistas invertir en estabilidad y progreso pactar

de la que te da calor cuando hay un titular que te sitúa en el ámbito mediático

quienes te han votado y quienes no lo han hecho elkarrekin podemos izquierda unida pide la devolución de unos presupuestos perfectamente alineados y en la misma sintonía y líneas de actuación

donde este grupo tiene responsabilidades de gobierno sea en irún

o sea en madrid para ser alternativa hay que ser creíble

cuando se pide una devolución de las cuentas que aunque no se compartan plenamente contienen las mismas herramientas que las de otros gobiernos donde sí se está presente desde el gobierno vasco se les propone en la oferta de negociación setenta y dos millónes de euros

y además compromisos en salud educación medio ambiente vivienda y empleo

en salud mental con subvenciones a empresas para acciones orientadas al control de emisiones también con inversiones en centros educativos y bonificaciones

sobre formación en nuevos nichos económicos para personas desempleadas nuevas plazas

compromisos en inclusión social en ayudas sociales para gastos energéticos en emancipación juvenil en política de transición hacia nuevos modelos de cuidados para mujeres migrantes y refugiadas en alquiler social en impulso del euskera y se planteaba además la reactivación de los noventa millónes de euros en dos mil veintiuno del fondo de sostenibilidad energética para los ayuntamientos vascos y la ruptura de la negociación abrió una oportunidad a otro grupo parlamentario euskal herria bildu que ha concluido con un acuerdo presupuestario que ha supuesto

la utilidad del ejercicio de la política del acuerdo y del diálogo lo que sin duda redunda en beneficio de la sociedad vasca porque qué se puede

si no se acuerda con este gobierno hay otra manera en las políticas públicas y como su enmienda a la totalidad es extensa yo voy a intentar explicar el rechazo de los socialistas vascos a los planteamientos que en ella

en lo que respecta a los ingresos bien por fiscalidad fondos europeos o endeudamiento yo sí quiero dejar claro más allá del compromiso de una revisión de la fiscalidad que nuestro sistema fiscal es un sistema progresivo no es un sistema regresivo que los fondos europeos vinculados al plan de recuperación

tienen un mecanismo de incorporación y gestión presupuestaria en el capítulo cinco en los artículos del veintiséis

de la ley de presupuestos y respecto al endeudamiento la tasa de referencia del objetivo de déficit es la cifra pactada en la comisión mixta del concierto económico y por tanto

si queremos ser rigurosos y no a añoranzas de lo que hubiera podido ser y que por cierto es una tasa de referencia mayor que en otras comunidades autónomas de régimen común y además contamos con el reconocimiento del objetivo de déficit para las diputaciones forales estos son los mimbres con los que hay que planificar los ingresos

basada en la utilización rigurosa de los recursos públicos y la sostenibilidad de las finanzas públicas procurando también el cumplimiento de los límites de déficit y de deuda que se acuerdan en la comisión mixta del concierto en cuanto al capítulo de gastos que elkarrekin

izquierda unida proponen los socialistas sí queríamos dejar claro primero

pretenden el relanzamiento económico de euskadi y uno de sus ejes principales es la propuesta

lo que supone un incremento de ese cincuenta por ciento más del capítulo de inversión

ha reconocido segundo en el ámbito de la salud y lo decía en mi intervención anterior

lo que supone un incremento del cuatro por ciento destacando el capítulo dos que crece un tres coma uno por ciento y que corresponde

un cuatro coma dos por ciento en una apuesta decidida por el ámbito sociosanitario de modo que la atención sociosanitaria se incrementa un trece coma nueve por ciento y no podemos pasar este ámbito sin lamentar esa ruptura de la negociación que proponía incrementar

y realizar los cambios organizativos para garantizar las consultas presenciales y disminuir listas de espera en los centros de salud

incluso de los servicios de salud bucodental en colaboración con el ministerio de sanidad ampliándola a menores entre cero y seis años a mujeres embarazadas a personas con discapacidad y a personas en procesos oncológicos además de los incrementos presupuestarios para el ámbito de la salud mental con apertura de nuevos recursos tercera cuestión en materia de trabajo y empleo minimizan ustedes el objetivo de empleo por debajo del nueve coma cinco por ciento a pesar de que en agosto de dos mil veinte alcanzamos el pico de desempleo

y cuando las previsiones apuntaban elevadísimas tasas de desempleo

encontrándonos en niveles incluso previos a la pandemia en la mayoría de sectores

de hace más de una década el ritmo de recuperación fue más lento en cuanto a la calidad del empleo que se genera aún es débil es verdad por la alta temporalidad y la parcialidad no deseada y ambos asuntos se intentan atajar dentro del marco competencial que corresponde en la mesa de diálogo social que dirige el ministerio de trabajo para conseguir el acuerdo de un nuevo marco laboral

así nos hemos pronunciado los socialistas vascos en las diversas iniciativas que hemos debatido en este parlamento

se ha diseñado la estrategia vasca de empleo dos mil treinta con participación de agentes sociales y con el debate monográfico celebrado a petición propia por el departamento de trabajo y empleo

es el gran suelo la gran base que orientará todas las acciones en materia de empleo para casi toda una década y los socialistas vascos a diferencia de ustedes

como clave para la defensa de las personas trabajadoras y el progreso de las empresas la actitud del departamento de trabajo y empleo en los conflictos laborales es la del respeto a las mismas y el permanente contacto con comités y empresas

los puntos de acuerdo y si las partes lo deciden también suscribir las soluciones otro elemento que me parece que elkarrekin podemos izquierda unida quiere confrontar

que en euskadi fue ejemplar facilitándose todas las vías para garantizar que esa red se extendiera en el tiempo con fórmulas ágiles

desconocen ustedes los acuerdos de la mesa de diálogo social en euskadi que es la que fija cuantías plazos de resolución y máximos de ingresos los complementos han sido menos de los calculados en el peor momento de la crisis porque hemos sabido resistir y recuperar la actividad económica

energía de la prevista euskadi ha sido la única comunidad autónoma que ha atendido a todos y cada uno de los casos de quienes cumplían los requisitos y se sigue tramitando expedientes vivos durante seis meses por decisión de esa mesa de diálogo social y se mantiene

el mantra del recorte obvia la realidad las cuantías se han incrementado estos tres últimos años

su reforma se ha presentado públicamente se ha explicado a los grupos ha pasado por un proceso de participación se ha valorado por el consejo económico y social de euskadi

por parte de la cojua y del órgano de coordinación económico de control económico lamento que elkarrekin podemos izquierda unida no aceptara el incremento de dos millónes en la convocatoria

de nuevos nichos de empleo para personas desempleadas que no aceptará la nueva línea subvencional de dos millónes de euros enfocada al mentoring en los programas lehen aukera y de fomento de empleo juvenil

vinculada al fomento del contrato relevo para no perder conocimientos por jubilaciones o el incremento de cuatro plazas adicionales en la inspección de trabajo

ninguna renuncia a la implementación del derecho subjetivo a la vivienda se da cumplimiento al mandato legal como no podía ser de otra forma respecto

se han incrementado hasta los doscientos setenta y cinco euros al mes

y lamento también en este caso la ruptura de la negociación y que no aceptarán un incremento de cinco millónes de euros en la compra de vivienda pública para alquiler social que no aceptaran la culminación del desarrollo reglamentario de la ley de vivienda con especial atención a la aprobación del decreto del derecho subjetivo de vivienda con las modificaciones presupuestarias necesarias para su puesta en marcha

en el órgano de coordinación tributaria medidas fiscales para contener los precios del alquiler y plantear un sistema de control de precios en alquiler privado cuando la ley estatal lo permita en educación ustedes rechazaron también en la negociación incrementar ocho millónes de euros el plan de inversiones para cubrir patios de centros públicos y disponer de un millón de euros para reducir un quince por ciento las cuotas de las matrículas en educación de cero

en energía respecto a la creación de la sociedad pública de energías renovables disponemos en euskadi desde mil novecientos ochenta y dos de una agencia energética el ente vasco de la energía que a lo largo de las décadas ha ido teniendo un papel fundamental en la evolución del sistema energético vasco

como en su participación en proyectos energéticos estratégicos para el país constituyendo además un referente reconocido a nivel estatal e internacional y han rechazado en su estrategia

en políticas sociales han rechazado el compromiso plurianual de once millónes casi once millónes y medio de euros para impulsar proyectos vinculados a la inclusión social de los colectivos y personas en riesgo de exclusión han rechazado el incremento dos millónes de euros en aes para gastos de energía o combustibles de uso doméstico han rechazado ochocientos mil euros para diagnósticos y planes de emancipación juvenil municipales

sobre envejecimiento y longevidad para dinamizar la política de transición

han rechazado la mejora de las instalaciones del centro de acogida de personas migrantes y refugiadas de oñati esa fue esa ha sido su decisión y la coherencia en política es un valor demasiado despreciado los socialistas hemos sido coherentes en lo que décimos y en lo que hacemos

útiles a la sociedad vasca los socialistas hemos sido criticados por las políticas de acuerdos entre diferentes para hacer políticas progresistas en las que empezamos a implicarnos hace ya mucho tiempo en euskadi y que recuperamos hace ocho años siendo hoy una marca de agua de otros lugares desde nuestros ayuntamientos

y en el gobierno de pedro sánchez y por coherencia por compromiso porque cumplimos nuestra palabra y porque es lo mejor para la ciudadanía vasca vamos a rechazar
la solicitud de devolución de estos presupuestos que plantea elkarrekin podemos izquierda unida gracias eskerrik asko corcuera andrea

que yo sepa no estamos en campaña electoral faltan dos años y medio para las elecciones pero quién diría escuchando sus intervenciones y leyendo la enmienda a la totalidad que tiene artillería eh esa es su estrategia si realmente aspiran a gobernar deberían colaborar no generar tensiones ni alarmas porque hoy señora gorrotxategi en un tono muy suave pero

mentiras con las cifras presupuestarias de que este presupuesto decrece con los ingresos desfasados de ese presupuesto no sé si usted me ha escuchado

en la primera intervención en la que hemos justificado la presupuestación de estos ingresos

sigan con sus dogmas y sus demagogias con sus mentiras y con su crítica sin argumentos

que una oposición responsable no haría esto sino controlar

y también apoyar creo que confunden la crítica constructiva con la descalificación y la intransigencia porque todos y todas somos necesarios y ustedes también

han tenido una magnífica oportunidad para el acuerdo para dejar los vértigos políticos a un lado

pero nos han llevado a nosotros a la decepción política y creo que esta es la definición

y no con la de este gobierno vasco que está más en la valentía rompieron las negociaciones unilateralmente enviando un mensaje al consejero ocho minutos antes

una política muy mediática y poco coherente saben que este presupuesto es mucho más social que el de comunidades en las que ustedes gobiernan mucho más social que los presupuestos generales del estado donde nuestro grupo tras una intensa y sincera de negociación

una política que en euskadi podemos ha aparcado podían ser tan exigentes en madrid como lo son aquí pero no no han querido estar a la altura que el momento exige pero aun así he de decirles que este grupo euzko abertzaleak y este gobierno seguirá con la mano tendida y no perdemos la esperanza de que en próximos ejercicios desde podemos puedan afrontar la negociación presupuestaria de forma seria y con franqueza más aun viendo

y me explico indican que es un presupuesto que no garantiza la recuperación y la prestación de servicios de carácter social eso lo dice el texto de su enmienda cierto

los presupuestos de la inversión y también de la oportunidad de incorporar los recursos procedentes de europa

y trabajen para lograr el mayor volumen de fondos europeos porque entonces sí estarán empujando y haciendo que esta sociedad progrese y le recuerdo la respuesta a los tres proyectos estratégicos remitidos a la señora calviño el viernes preguntaremos al consejero por ello

o en el reparto para la creación de nuevas plazas cero tres años gratuitas que euskadi se queda fuera al disponer de plazas suficientes creadas con recursos propios necesitamos unos criterios de reparto adaptados a nuestra realidad utilicen su influencia al servicio de esta sociedad

y de su desarrollo segunda pata la pata de los servicios sociales hay que tener valor para ensalzar como hizo pilar garrido los presupuestos generales del estado y descalificar los vascos aquí

contamos con el sistema de protección que destina más recursos a las personas y en especial a las más vulnerables nos medimos con los países más avanzados de europa y usted con este discurso endeble y carente de rigor no hará falta que le recuerde que sus compañeros copian nuestras políticas sociales allá donde gobiernan

mejorar siempre y ahí se incardina este proyecto llegar a toda persona que lo necesite no dejando a nadie atrás pertsonak zaintzea eta babestea pertsonak

primero índice de desarrollo de los servicios sociales dos mil veinte realizado por la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales que

y concluyen que euskadi cuenta con los servicios sociales más capacitados del estado somos junto a navarra la única comunidad que ha obtenido una calificación de excelente

justicia y políticas sociales el noventa coma seis por ciento de la población vasca vive en situación de bienestar

el sistema por tanto funciona y cumple su objetivo de llegar a los colectivos más desfavorecidos

euskadi es la comunidad autónoma con la población menor de dieciocho años en riesgo de pobreza o exclusión con un trece por ciento siendo la media del estado un veintinueve coma cinco y en europa un veintiocho

y la conclusión es común en todos ellos nuestro modelo cohesiona combate la pobreza y desigualdades y se refuerzan año a año

porque esta política de justicia social y solidaridad representa una seña de identidad de este gobierno

la renta de garantía de ingresos que cuenta con un incremento del tres por ciento para el dos mil veintidós un aumento progresivo y constante históricamente pero una vez más insuficiente para ustedes

y dos lo importante no era el valor protector de la prestación y no su cuantía

pero aquí curiosamente se cuestiona su cuantía pero yo sí que me quedo con el valor protector

han sido muchas comunidades autónomas que nos han seguido pero ninguna ha llegado a alcanzar los niveles de cobertura y protección que tenemos aquí

demográfico o la transición o la transformación del modelo de cuidados también para la cohesión social y la igualdad igualdad de oportunidades

y este presupuesto avanza en ese camino actuaciones también para promover de vidas libres de violencia contra las mujeres dieciocho millónes o la consolidación del programa gizonduz aumentando su dotación para dos mil veintidós

de la mano de emakunde el reto de la estrategia contra la brecha salarial como ve muchos retos mucho trabajo al que este presupuesto pretende dar camino y hoy

es cuestión de prioridades y las de este gobierno y de partido nacionalista vasco están enmarcadas

un proyecto en el que han podido incidir porque el gobierno vasco les ofreció once coma cuatro millónes más para inclusión social dos millónes más para ayudas de emergencia social

es una verja con muchos pinchos y muchas puntas que hizo que incluso cuando acordamos con su coalición en dos mil veinte los presupuestos ustedes izquierda unida

en contra ejemplo de la intransigencia cerrazón que no entendemos

creo que la ideología debe servir como aspiración política pero no como limitante para construir un país este país en común y claramente su posición se justifica con su estrategia perpetua en izquierda unida y transitoria

pero todas estas cuestiones se están debatiendo en este parlamento en ponencia definiendo las bases del acuerdo para el pacto educativo vasco

me gustaría darles algunos datos la educación es y seguirá siendo uno de los motores esenciales de los presupuestos se destina el veinticinco por ciento del presupuesto tres mil doscientos treinta y cinco millónes de euros

eta honetan ere ezetza parte importante del presupuesto se dedica a las políticas de inclusión atención a la diversidad y necesidades educativas especiales sin olvidar

y a mejorar los comedores escolares con un diecisiete por ciento más de inversión que el año anterior eta lan guzti hau formakuntza eta ikerketa ahaztu gabe

eta azken atal bat energia solicitan crear una empresa pública de energía para generar y comercializar energía y así abaratar la factura energética

diciendo que no a esos proyectos de generación si no es generando comercializando pero cómo

nuestro grupo en madrid a su gobierno nuestro grupo le ha propuesto reformar usted bien sabe que esta empresa de energía que proponen no impulsa

y no es intención del gobierno vasco ser meros observadores ni de esconderse tras el argumento de que el precio de la energía compete a otros y ahí también les insto a la señora gorrotxategi y al señor hernández a que actúe su grupo en madrid

nos dan lecciones apuestan por lo verde lo renovable pero rechazan todo lo que este gobierno propone

nosotros y este gobierno partimos de que primero ahorro energético y después eficiencia energética y reducción de gases efecto invernadero cero emisión para dos mil cincuenta se aboga por una política europea común energética sabiendo que es muy difícil porque los modelos energéticos son absolutamente distintos

en noruega la hidráulica no son modelos comunes y es muy difícil un planteamiento común pero sí es más fácil una política de abastecimiento y reservas estratégicas una política energética común en europa

políticas energéticas que ayuden a las familias y ahí el trabajo de las administraciones ayudando a combatir la pobreza energética y política mirando a las empresas en una sociedad como la nuestra

que estamos cercanos a la patronal petronor enagas y citaban estas empresas y por supuesto

en tanto que trabajan por ejemplo en el proyecto de corredor de hidrógeno que impulsan por detrás y voy más allá

el plan de residuos en ocho años se ha reducido un diecisiete por ciento en generación de residuos la apuesta de reducir un treinta por ciento en diez años para dos mil treinta

los tres proyectos presentados a vicepresidenta calviño uno de movilidad

y en dos mil diecinueve el gobierno vasco asumió la declaración de emergencia climática de las primeras comunidades autónomas actitud comprometida estas políticas planes y estrategias han hecho posible que desde el dos mil cinco la economía vasca haya crecido un veinte por ciento mientras que las emisiones de gases efecto invernadero se hayan reducido un veintisiete por ciento

que animan a este gobierno a seguir impulsando un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo

la resiliencia del territorio y las energías renovables o los cuarenta y cinco millónes para el plan de economía circular y bioeconomía por todo ello creo sinceramente que estos presupuestos son unos buenos presupuestos que se enfrentarán a todos estos retos

ahí están los acuerdos que hemos alcanzado con todos los grupos con el partido popular con elkarrekin podemos y con bildu pero creo que queda suficientemente demostrado que los argumentos para defender hoy su enmienda a la totalidad y sobre todo con ese tono tan crítico empleado en su redacción

al hilo de las intervenciones de los cuerpos que sustentan el gobierno sí que quería hacer algunas apreciaciones

credibilidad ciertamente es absolutamente importante

qué hacíamos en otros lugares en los que tenemos cierta participación en el gobierno lo que podemos es verdad que hacemos lo que podemos

que el resultado sea exactamente igual al que reflejan estos presupuestos y por ejemplo datos

durante la pandemia cuántos van a ser cuántas plazas van a ser consolidadas en euskadi cero vamos a valencia por ejemplo allí donde estamos en cuyo gobierno tenemos alguna presencia la comunidad valenciana ha indicado que de los

se van a renovar seis mil cincuenta hay una diferencia entre cero y seis mil cincuenta por su parte

ha manifestado su intención de mantener el máximo personal posible formado durante estos meses

es decir también el departamento está trabajando para consolidar una plantilla que aquí un objetivo que aquí ni se vislumbra veremos

contratando a algunos de esos sanitarios con lo cual la credibilidad nuestra yo creo que quedaría manifiestamente probada como quedó por cierto cuando y la señora corcuera también hacía referencia

de más que proyectábamos de gasto en los presupuestos si nos atenemos al gasto de más presupuestario del anterior ejercicio fueron más de seiscientos millónes quiero decir que no debe ser tampoco tan

aspirar a un nivel de gasto de quinientos millónes más también

se anuda también con el concepto de la credibilidad la falta de rigor hombre rigor rigor no está para dar muchas lecciones

mensaje de los ocho minutos antes de la rueda de prensa desde luego esa rueda de prensa no fue para anunciar la enmienda a la totalidad eso no pasó

en esto que me está diciendo en aquella rueda de prensa lo que hicimos fue anunciar que presentábamos una proposición de ley para la creación de una empresa pública de energía y era nuestra vuelta de tuerca nuestra vuelta de tuerca para volver a sentarnos y para poder negociar con fuerza lo que habíamos planteado en la mesa anterior quien se despidió hasta el año siguiente

en fin falta de rigor también hablar de los seis euros ocho euros por habitante en gasto hombre pero es que si nos fijamos en las competencias que tiene atribuida cada administración cada

es que no tienen que ver las competencias en euskadi principalmente están en materia de educación y de salud

qué quiere entonces hacer comparar magnitudes incomparables

importante en cualquier caso y lo fundamental lo fundamental

de lo que consideramos que es un mal borrador de presupuestos es lo siguiente y es que estas cuentas no aseguran la recuperación desde nuestro punto de vista no lo aseguran y más además a la vista de la reciente evolución de la pandemia y creemos

además y para nosotros eso es fundamental creemos que estos presupuestos no van a poder reflotar unos servicios públicos que están ya muy castigados

al señor azpiazu hay materias que son acuciantes

intervenir con mucha con absoluta contundencia y bueno pues no es así y no es por nada pero no es de recibo

esta semana esté dejando de dar citas presenciales desandando un camino que a duras penas ya habíamos empezado a caminar miles de tratamientos visitas rutinarias curas han sido

en estos últimos dos años y ahora ahora con estos presupuestos era el momento de recuperar el tiempo perdido pero ya hoy es tarde y los datos de incidencia en esta comunidad autónoma en euskadi son

es un dato objetivo absolutamente riguroso se dan cuenta de que bajo su mandato

en peligro de retrocer de retroceder perdón cada vez más esta misma semana el consejero azpiazu estaba

entregando un premio a una empresa privada de salud que es

cuyo modelo de negocio por cierto se basa básicamente en que algunos de los problemas

de salud pública cronificados por gestión por mala gestión

el incremento por otra parte de la adquisición de alguna forma de seguro de salud en euskadi debido a esta cronificación de estos problemas de salud pública está por encima del treinta por ciento en algunas provincias vascas un éxito

merecer más bien que el premio no fuera de reconocimiento del gobierno a imq sino de imq al gobierno por el favor

a su negocio y sí yo creo que es una malísima semana esta para aprobar este presupuesto que se pretende porque precisamente los ámbitos en los que advertimos

mi grupo parlamentario advirtió que necesitaban cambios profundos de calado y estructurales precisamente en esos ámbitos hoy

en boca de todos no me gusta que esto sea así

que no fuera así pero es lo que está pasando la atención primaria está colapsando las trabajadoras de residencias están en lucha con servicios mínimos

todo esto todos estos ámbitos los habíamos puesto sobre la mesa y todo ello fue calificado como

de los vascos y de las vascas no son irreales estos son los problemas de la ciudadanía y le aseguro que no son irreales lo que es irreal es pretender un futuro mejor para euskadi con estos presupuestos

están bastante claras hay lugares en los que se están ensayando hay países que

apuestas presupuestarias expansivas claras y con un crecimiento un protagonismo creciente del sector público con más y con mejor

nosotras representamos un modelo político y social distinto todos igualmente legítimos el nuestro es distinto eso no es ningún

la negociación presupuestaria este gobierno tuvo la oportunidad de dejarse influir de adoptar algunas medidas progresistas de mejorar en algo unos presupuestos que se muestran evidentemente

seguir haciendo política de cara a la galería intentando aparentar una actitud dialogante

los socialistas vascos lamentamos la vuelta al vértigo político de elkarrekin podemos izquierda unida la legitimidad de la discrepancia se puede entender también la crítica política y el posicionamiento contrario a unas cuentas pero mire plantear que el proyecto de ley de presupuestos de euskadi para dos mil veintidós no está a la altura del momento histórico

tan maximalista y tan encorsetada que resulta realmente una política absolutamente inútil para la ciudadanía desde la oposición no se gobierna señora

pero sí se puede participar en las políticas que sirvan a la ciudadanía se puede influir en las decisiones

complejos reforzar nuestros servicios públicos crear empleo y que este sea de calidad y garantizar políticas sociales para que nadie quede atrás avanzando en una recuperación justa requería requiere el esfuerzo de todos

a todos nos correspondía comprometernos con el país en un momento tan delicado como este y hacerlo además con altura de miras y además con responsabilidad y los socialistas vascos creemos que elkarrekin podemos izquierda unida no ha estado a la altura

o de estrategias partidistas que impiden avanzar e impulsar las soluciones a los retos que nos llegan y que comprometen a las generaciones futuras mire

de los que más tienen no son unos presupuestos timoratos ni escasos y desde luego quinientos millónes de euros de su oferta

en la negociación no es ni un modelo alternativo ni política ni socialmente no es un modelo alternativo cuando estamos hablando de unos presupuestos de trece mil ciento ocho millónes

estos presupuestos responden a dos asuntos su base el acuerdo de gobierno y el programa de gobierno esto es lo que está contenido y si realmente elkarrekin podemos izquierda unida hubiese querido influir

como bases para salir de la crisis sanitaria para recuperar la economía y el empleo

lo hubieran podido hacer pero ustedes se mantuvieron impertérritos con su propuesta no avanzaron nada y prefirieron dejar refuerzos

validaban en su propuesta para decir no y luego les pega un ataque de celos porque dejan abierta la puerta de la estrategia política a euskal herria bildu y a ustedes les entra ese ataque de celos y ahora justifican en una enmienda a la totalidad

su panorama y estrategia política porque han tenido que dar un paso atrás claro se han tropezado

torpes en su estrategia política cuando han tenido sobre su mano poder influir pero bueno legítimamente están ustedes

lo que ustedes consideren conveniente pero no digan que estos presupuestos no atajan necesidades ni urgencias porque eso es mentir eso es mentir lo han hecho estos presupuestos

y urgencias en el dos mil veintiuno y lo siguen pretendiendo en el dos mil veintidós los presupuestos plantean los estímulos necesarios además

que haga posible esa salida de la crisis sanitaria y económica y su enmienda a la totalidad y su portazo a la negociación presupuestaria

a medidas que la propia coalición de elkarrekin podemos izquierda unida

en sus propuestas y suponía reforzar las políticas y acciones del gobierno vasco contempladas en esos presupuestos de euskadi para dos mil veintidós

su responsabilidad con estrategias maximalistas los socialistas vascos estamos para sacar estos presupuestos adelante para gestionarlos con el mayor acierto con la máxima responsabilidad

nuestro compromiso de gobierno garantizar la salud de la ciudadanía la recuperación económica y del empleo sin dejar a nadie

y que le diga su compañero el señor hernández lo que ayer se comentó en la comisión de salud respecto a la contratación de plantilla

que él sí estuvo presente en dicha comisión y otra cuestión señora

compare proyecto de presupuestos con proyecto de presupuestos nunca compare un proyecto de presupuesto con una liquidación presupuestaria

porque estará mezclando asuntos que luego llevan a errores muy importantes nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea berrojalbiz andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea si le soy sincera no entiendo su postura en aquellas propuestas como la entidad de energía el pacto educativo y la contratación de cuatro mil trabajadores en osakidetza

datos argumentos que soportan lo innecesario de sus planteamientos pero como veo que insisten me voy a detener en este último tema de los recursos de osakidetza porque me parece relevante recursos en salud

los necesarios para garantizar y reforzar un sistema de salud público universal gratuito y de calidad recursos que obtenemos de nuestro sistema fiscal progresivo

a un sistema tributario que cada vez más recuerda al del antiguo régimen cuando la nobleza no pagaba impuestos usted cree que esto es serio cuando en euskadi se tributa por el impuesto sobre el patrimonio cuando el tipo marginal del irpf es del cuarenta y nueve por ciento

cuando hay una tributación mínima en el impuesto sobre sociedades que ustedes en el estado diez años después han copiado no

notarekin y miren lo poco fundamental que está su propuesta

la solicitud que hacen de formación que exigen para la ertzaintza en materia de derechos humanos

setenta y seis páginas del material de los cursos formativos en temas de derechos humanos

para dos mil veintidós sesenta mil euros para un nuevo convenio de formación en esta materia con la upv y aun siendo esta la realidad

y en aquello que ustedes planteaban mejorar este gobierno les hizo una oferta treinta millónes más para reforzar osakidetza la salud bucodental la salud mental cinco millónes más para alquiler social quinientos mil para avanzar en la gratuidad para

y más medidas que abarcaban sus propios planteamientos pero que su grupo no tuvo la valentía de acordar por qué

que perdón no fueron ocho porque no fue en la rueda de prensa fue un par de minutos después vale

pero tampoco viendo la oferta realizada por el gobierno sobre sus planteamientos y tampoco viendo cómo crece este gasto

respecto el presupuesto que ustedes apoyaron en dos mil veinte cuando las tasas de referencia de deuda y déficit han sido negociadas con su gobierno y se han exprimido al máximo

que por cierto instan a ello pero luego en una enmienda parcial colisiona con la reducción de cincuenta millónes que exigen para finkatuz

expansivo inversor y anticíclico defínamelo usted puedo esperar su respuesta en el debate del veintitrés y más con estos mimbres

con un presupuesto que invierte mil seiscientos millónes de euros cómo se puede decir que euskadi se desmorona

la forma buena de construir país es la vía del auzolan de la cohesión comunitaria

se resuelven cada día cooperando unos con otros valores

si en esta institución han sido capaces de poner por encima de todos los intereses a la ciudadanía por qué aquí no han realizado ese mismo ejercicio de responsabilidad y realismo creó eta amaitzeko legebiltzarburu andrea creo que hay muchas cosas en común que se podían haber trabajado

todos esos valores que ustedes defienden tienen su reflejo en este proyecto

y a ser verdaderamente conscientes de su soledad o más bien de los compañeros de viaje que han elegido para rechazar este presupuesto

les ánimo a que en próximos ejercicios se muevan salgan de ese encuadre y colaboren con nosotras y nosotros para hacer de euskadi

eredu bat behar dugulako desde luego este presupuesto sigue

este país para afrontar el futuro con garantías pero hemos conseguido desde euskal herria bildu hemos conseguido que sea mejor que el proyecto original del gobierno

exigen afinar los diagnósticos establecer prioridades claras cambiar las formas de hacer política

y no enredarnos continuamente en polémicas absurdas

exigen creer realmente en nuestro país y en su futuro eta bai azpiazu jauna borondatea baldin badago akordioak lortzen dira hori da guk uste duguna hori ere guk uste dugu y por primera vez en muchos años vemos que el gobierno vemos que el partido nacionalista vasco y el partido socialista parecen

quizás sea solo un destello porque aún vemos actitudes como la ley tapia o tantas declaraciones de este gobierno

que el gobierno comienza a entender cómo se debe afrontar el futuro aurrekontu hauek esan dudan bezala onartuak zeuden lehenengo egunetik